gazteleraz la llamada de lakua a subir sueldos choca otra vez con la resistencia de la patronal aquí

al día siguiente de que un portavoz de este gobierno diga que hay que subir los salarios no salen los sindicatos no sale ningún otro agente socioeconómico a decir que no hay que hacer eso sale la patronal y por tanto es hora de llamar a las cosas por su nombre en este país quien no quiere que suban los salarios es la patronal a quien hay que hacer los emplazamientos para que suba los salarios es la patronal y más concretamente confebask una organización que se está conformando con ser la rama

y si me apuras todavía ni eso porque vistos los últimos movimientos en el estado español en torno a la negociación colectiva y a la subida del salario mínimo interprofesional

está pasando a confebask por la izquierda de la misma forma por otro lado

por la izquierda a este gobierno incluso sabemos y se nos dirá una vez más que son los agentes sociales a través de la negociación colectiva los responsables de la subida salarial y efectivamente desde un punto de vista técnico eso es así

pero desde el punto de vista político se puede y se debe hacer mucho más desde el gobierno y también se debería haber hecho mucho más desde esta cámara porque evidentemente adelanto ya que la propuesta de eh bildu no cuenta con el respaldo de los grupos que sustentan al gobierno se puede y se debe hacer mucho más para que suban los salarios incluso un periódico como el país que está evolucionando a marchar forzadas todos sabemo s

esta misma semana editorializaba el martes al respecto de la subida del salario

con todo la subida anunciada se queda corta en más de un sentido debería ser mayor por supuesto pero el problema principal es que se necesita además

impulsado políticamente por el gobierno para subir los salarios en convenio de forma estable durante los próximos años el ejecutivo tiene recursos para impulsarlo si así lo desea por más que la negociación sea entre los agentes sociales se refiere evidentemente al ejecutivo central pero

al ejecutivo vasco no está en su mano mediante decreto

presionar de forma más efectiva a quien no quiere subir los salarios para que efectivamente los suba porque yo creo que no hace falta repetir

incluso en cuestiones de carácter técnico en el sentido de que la economía necesita salarios crecientes para poder generar más demanda esto se dio cuenta y es que ya digo no estoy mencionando aquí a grandes pensadores de la izquierda ya

suficiente como para comprar un coche a quién se lo iba a vender es algo tan absolutamente elemental

más conservadora pero es que además de ser necesario para el buen funcionamiento de la economía la subida generalizada de salarios requerimiento moral y político de primer orden porque la riqueza que se genera en esta sociedad

en el año dos mil ocho cada vez se queda en menos manos porque no se reparte ni a través de los salarios ni a través de los impuestos y además vamos hacia atrás como hemos visto con la última reforma regresiva

más asertividad más fuerza más decisión a la hora de emplazar a la patronal y es cierto que también claro cuando vemos cómo se comporta el gobierno cuando a ellos le toca ser patronal pues lógicamente ahí es donde nos entran las dudas porque un gobierno que ha sido artífice de

entre los funcionarios y funcionarias no ya del cuatro coma ocho o del ocho coma cinco por ciento como ha sucedido en el conjunto de los salarios sino del quince por ciento

un gobierno que vende como un éxito una hipotética subida salarial para este año que sigue consolidando

un gobierno que sale en absolutamente todas las fotos con la patronal en absolutamente todos los eventos

pues lógicamente pocas expectativas podemos tener sobre su capacidad de que presione

por qué están los salarios congelados por qué están las pensiones congeladas

por qué las tasas de reposición bloqueadas impiden contar con los funcionarios y funcionarias en un número suficiente por qué

a las necesidades reales de nuestra economía por qué nos han liquidado las cajas podía seguir la lista pero se acaba el tiempo porque se decide en madrid se decide fuera de aquí

importante sobre el futuro estatus de este país y algunos quieren establecer una dicotomía entre las cosas de comer y los marcos de decisión entre las cosas de comer y el derecho a decidir las cosas de comer tienen muchísima relación con qué se decide con quién decide

y con dónde se decide porque estamos convencidos y convencidas de que la correlación de fuerzas y la propia estructura

nos llevaría a tomar unas decisiones muy distintas y mucho más favorables para una mayoría social de este país si tuviéramos capacidad de regular de administrar aquí nuestros propios recursos y las normativas que hacen referencia a la economía desgraciadamente hoy el gobierno y los partidos que sustentan al gobierno se van a volver a poner de perfil ante una problemática tan grave como la de los salarios van a volver a actuar de escuderos de la patronal y es que

entre otras cosas porque la diseñan ellos que impone la política fiscal al gobierno y que se regocija al contemplar cómo el gobierno

mientras está hundiendo los salarios ya hemos visto en este gobierno bipartito qué es lo que ha cedido cada cual

en sus propuestas de izquierda y el pnv ha moderado sus propuestas de afirmación nacional por eso la patronal está contenta

legebiltzarkideok a nuestro grupo parlamentario le parecía que esta iniciativa que traía en este caso el grupo eh bildu

no solo por los contenidos en su mayor parte en la parte fundamental estamos sino que oportuna precisamente por algo a lo que se ha hecho referencia a que hace apenas unos meses este parlamento aprobó una moción

la necesidad de las subidas de los salarios una iniciativa ante la que mi grupo se abstuvo por considerarla insuficiente entre otras cosas porque considerábamos

a la patronal como beneficiaria de la actual situación de empobrecimiento de la clase trabajadora y como motivadora de las reformas

nosotros estamos de acuerdo fundamentalmente con el contenido de la iniciativa que se propone estamos lógicamente de acuerdo con la necesidad

en los últimos años desde el año dos mil diez las rentas del trabajo han perdido cinco puntos en su peso respecto al producto interior bruto

mayor diferencia cuatro puntos respecto a la subida del ipc han subido cuatro puntos por debajo de media que lo que ha subido el ipc y estamos de acuerdo también

de la patronal de confebask y del conjunto de las patronales porque son como decía responsables de la situación porque son

del mundo laboral de los últimos años cada vez que va a salir o que se prevé una reforma laboral si queremos saber cómo va a ser esta o en qué sentido se van a aprobar sus medidas solo tenemos que echar un ojo a los documentos que promueven que sacan las fundaciones vinculadas a la patronal

antes y ahí encontraremos cómo van a ser las futuras reformas laborales y estamos también de acuerdo en la necesidad de un nuevo marco de relaciones laborales aunque nosotros tenemos un punto de vista diferente y pensamos que sobre todo lo fundamental donde nosotros creemos que hay que poner el foco

de ese marco de relaciones laborales fundamentalmente un marco de relaciones laborales que esté al servicio de los trabajadores no un marco de relaciones laborales supuestamente imparcial para que diriman entre ellos las diferencias porque en el actual sistema capitalista

a favor de la patronal y por lo tanto el marco de relaciones laborales en nuestra opinión

trabajadoras y trabajadores puedan hacer una defensa real y efectiva de sus derechos y compensar esa relación de poder inherente a nuestro sistema

que la actual situación de empobrecimiento de la clase trabajadora de pérdida de poder adquisitivo en los salarios de las y los trabajadores no es una situación

es una situación que se ha posibilitado gracias a la imposición de medidas y reformas de manera deliberada y que no buscaban

sino que utilizaban la crisis como escusa para posibilitar una nueva situación

hoy en día donde los trabajadores estén en una situación de debilidad y donde el capital pueda mantener sus tasas de beneficio a costa del empobrecimiento del coste de la mano de obra

estas reformas y esta situación para quedarse ni la recuperación económica ni la superación de la crisis traerán

y de la capacidad de poder adquisitivo de las y de los trabajadores habrá que pelearlo y por lo tanto nos parece importante que los parlamentos y los gobiernos

de las y los trabajadores por eso nosotros presentábamos una enmienda a la totalidad una enmienda completa donde señalábamos una serie de cuestiones que nos parece que identificaban bastante bien y de manera extensa cambios que hay que hacer y que creemos que se pueden hacer en este momento desde este ámbito autonómico en primer lugar creemos importante seguir manteniendo la crítica a las reformas laborales no porque se haya convertido en un mantra de la izquierda

sino porque esas dos reformas son la principal herramienta de la que se ha dotado la patronal para poder ejecutar los cambios que nos han llevado a esta situación han incidido directamente en los salarios

la rebaja a treinta y tres días una incidencia directa y de una incidencia indirecta a través del debilitamiento de las posiciones de los sindicatos en la negociación colectiva entre otras cosas a través de la pérdida de la ultra actividad

recordamos que fue posible también gracias a la abstención del pnv

señalarlo nosotros proponemos también cuando hablamos de subida de salario indicamos que hay que subir los salarios un tres por ciento de media no es una cifra que nos inventemos nosotros es una cifra que está vinculada al crecimiento económico actual y previsto es la cifra necesaria para poder empezar a revertir la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores y proponemos que nos pronunciemos claramente por un salario mínimo de mil doscientos euros que tampoco es una cifra que se invente parlamentario es una cifra que supone el sesenta por ciento del salario medio en euskadi actualmente el salario mínimo interprofesional en euskadi se sitúa muy por debajo de esta cantidad supone solamente el treinta por ciento

por lo tanto no nos lo inventamos es una cifra óptima y además es una cifra realizable porque algunos dirán que no tenemos competencias para establecer un salario mínimo interprofesional y es verdad pero hay herramientas para establecer un salario mínimo en euskadi

si este elemento fuese aceptado en la negociación colectiva se podría perfectamente establecer en los convenios colectivos que el salario mínimo aceptable en euskadi

y que por debajo no estamos ante un salario digno para las y los trabajadores proponemos además una política salarial solidaria importante esta cuestión hay que aumentar porcentualmente los salarios más bajos porque en estos años ha aumentado la desigualdad también entre los salarios más bajos

más altos la diferencia entre los salarios más bajos y los más altos en euskadi ha aumentado cuatro puntos en los últimos años esta además es una medida

como bien se vio cuando compareció aquí el consejo de relaciones laborales los sectores más precarizados también salarialmente son los sectores más feminizados y por lo tanto una medida solidaria donde aumente porcentualmente los salarios más bajos es una medida también encaminada a la igualdad

porque esta desigualdad de género se ve muy explícitamente precisamente en el mundo del trabajo donde las mujeres siguen teniendo salarios

planteamos además una política de sueldos

que el gobierno apueste por incentivar una política de sueldos altos esta es una medida puramente economicista si quieren ustedes porque está basada

esa posición que tienen las patronales que ven los sueldos simplemente como una carga cuando en realidad los sueldos en el sistema en el que vivimos son absolutamente

ha dicho también antes para mantener o aumentar la demanda porque una economía no se podría sustentar si no hay demanda interna y las demandas

los trabajadores con sus salarios planteamos también otras series de medidas

para parar el descenso de los salarios en las situaciones de empresas en crisis y planteamos también la necesidad de vincular las subidas de los salarios a las empresas que trabajan con la administración pública y eso está perfectamente

por lo tanto nosotros planteamos una serie de medidas que son realizables y que nos parecen importantes más allá que hacer llamamientos a la patronal porque sabemos que la patronal

hay que presionarla y es muy importante y esta es la parte que nos parece muy importante para que la patronal acepte subidas salariales es muy importante cambiar los marcos de relaciones y volver a dotar a las y los trabajadores de herramientas para compensar la situación de desigualdad la situación

donde la patronal tiene siempre una situación de fuerza con respecto a las y los trabajadores nosotros como decía vemos con buenos ojos la iniciativa presentada pero hemos presentado una iniciativa que nos parece más completa y que nos parece necesaria

muchas gracias señora presidenta hombre yo no conozco a nadie que no quiera que le suban el sueldo y

no le he visto a nadie renunciar a parte de ese sueldo porque lo considere muy alto por lo tanto son todo el mundo está de acuerdo en que hay que subir los sueldos

hace poco tiempo y yo no sé si lo vamos a seguir teniendo como nos han amenazado algunos cada trimestre o cada

ahora yo creo que todos somos conscientes de que los salarios en españa se deciden por acuerdos entre sindicatos y patronales en la negociación colectiva he oído a los dos portavoces anteriores quejarse mucho de que

yo no sé si se niega tanto como ustedes dicen yo sí he visto algunos sindicatos que se han negado a negociación colectiva y no colectiva o sea no acudir a ninguna mesa de negociación

esta es una función específica de los agentes sociales tanto de sindicatos como de patronal no es una función de este parlamento no es nuestra función por otro lado las funciones que sí puede tener la administración a la política que subió el salario mínimo

para subir el salario mínimo y que en el dos mil veinte llegue a los mil euros en doce pagas

también subirán ahora bien esto de decir que todos los salarios tienen que subir señor hernández y que nunca pueden bajar

en este discurso de ambos dos yo he echado en falta la mención a los parados

ahora digamos que se pueden tomar más medidas mejores para mejorar salarios porque el empleo está creciendo

y entonces hay más margen ahora bien seguimos teniendo mucho paro entonces a mí que se nos plantee hoy como se nos está planteando

incluso en empresas en crisis no se pueden bajar los sueldos en una empresa en crisis lo que hay que salvar es la mayor cantidad de empleo posible o por lo menos es lo que algunos desde hace mucho tiempo planteamos

cómo que no se pueden bajar los sueldos pues si hay que bajarlos habrá que bajarlos y de hecho los sindicatos

y los conocemos todos entonces qué planteamiento nos están haciendo ustedes

esta de sueldos altos pues la política de sueldos altos nos parece a todos muy bien el tema es quién los paga

supongo que será a costa de que le incrementen la factura al gobierno vasco

con los impuestos de todos con los que se mantienen esos sueldos altos claro

estas cosas que nos están planteando y yo no me voy a extender mucho más porque ya le digo yo creo que todo el mundo estará a favor de que se suban los sueldos no conozco a nadie que esté en contra de que le suban el sueldo

ahora lo que nosotros no vamos a hacer en ningún caso es decirles

qué tienen que pactar en sus convenios colectivos que es lo que se nos ha propuesto hoy aquí ustedes nos dicen que en el convenio colectivo tienen que figurar determinadas cosas oiga esa no es nuestra función

o vamos a saltarnos a los sindicatos y a la patronal y lo que se nos está planteando es que desde este parlamento se diga cómo son los convenios colectivos lo que tienen que decir lo que tienen que hacer ese es el planteamiento que nos están haciendo y que el gobierno vasco se dedique a hacer esas cosas pues nosotros no lo vemos y señor casanova

porque el ejemplo más palpable es lo que ha ocurrido en cataluña con las cosas de comer

porque no se han tenido en cuenta a los ciudadanos a todos los ciudadanos catalanes y se han primado otras cosas y cuando ocurre eso pues ocurre lo que ha pasado en cataluña

y ya vamos a ver los sueldos en cataluña el empleo en cataluña cómo queda después

esta juerga que han tenido algunos durante dos años y desde luego nosotros evidentemente

y sí somos partidarios de lo contrario que es de la estabilidad de crear empleo

y otras no podrán subirlo tanto y otras a lo mejor para mantenerse los tienen que bajar entonces aquí venir con la generalidad de que hay que subir todos los sueldos un tres por ciento

que las hay y habrá otras que ya les gustaría poder subir el tres por ciento

o el uno y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer aquí es en fin un poco de realismo y ayudar a que a las empresas les vaya mejor y que cada vez haya más empleos

porque en eso creo que estamos todos de acuerdo pero es que esto no es una cosa genérica no estamos en cuba en cuba

los cien euros al mes que cobran los médicos pero aquí esto no funciona así gracias a dios y gracias a que todos los demás hemos conseguido que eso no ocurre y esperemos que no ocurra nunca

nos gustaría que los agentes sociales todos entiendan que tienen todo el apoyo político e institucional para buscar ese entendimiento sobre la protección de los derechos sociales que son una demanda de los trabajadores y las trabajadoras pero que son también un factor que va a beneficiar a empresas por su competitividad

respaldamos termine de abrir las puertas a la mesa de diálogo social con la foto completa

cuanto antes porque lo necesitamos me imagino señor casanova que le suenan estas palabras porque es como terminé mi intervención el pasado mes de mayo cuando usted presentó una moción relativa a la negociación colectiva

entre el partido nacionalista vasco eh bildu y el partido socialista para que este parlamento se pronunciara sobre la necesaria subida general de los salarios que compensara la pérdida de poder adquisitivo que las personas asalariaras han sufrido

y señor casanova a nosotros no nos caduca ni el valor de la palabra ni las cosas que pactamos y ya sé que los acuerdos no son para meterlos en una urna pero tampoco para dinamitarlos y nos ha parecido que el acuerdo que adoptamos en aquel momento y que nos costó llegar a él era un acuerdo que era oportuno que era adecuado

y usted nos decía en mayo en su intervención que había llegado a un acuerdo sin ningún tipo de complejo dice hemos llegado a un buen acuerdo porque existía la posibilidad de llegar a un buen acuerdo y eso que usted en ese momento creía que no era posible por eso no entendemos muy bien por qué ha llegado nuevamente esta iniciativa otra vez de forma unilateral

de aquel acuerdo y ahora presenta esta moción entonces yo me pregunto qué ha pasado de mayo hace escasamente siete meses a hoy porque de mayo aquí no han descendido más los salarios todo lo contrario ayer conocíamos usted hoy no lo ha dicho sigue haciendo referencia a los indicadores que utilizó el día de la interpelación

y que dejaba como titular de prensa ese que a usted le gusta traer aquí en recortes que los salarios vuelven a subir en euskadi y que lo hacen a su mayor ritmo desde dos mil trece

hasta en el sector servicios y de mayo aquí ha habido también más acuerdos laborales se han cerrado

que este año hay un quince coma veinticuatro por ciento más de personas cubiertas por convenios colectivos

el gobierno ha multiplicado las llamadas a que se siga por esta senda porque se comparte la necesidad que manifestó ya este parlamento de una subida general de los salarios y así se lo expresó también el señor consejero azpiazu en la interpelación de la que procede esta iniciativa

qué ha pasado desde ese pleno de mayo hasta ahora y lo único que soy capaz de intuir es que alguien le ha dicho desde su atalaya que ese acuerdo no le gustó

no vale y eso es lo que ha pasado yo eso es lo que le pregunto eso es lo que ha pasado que en esa atalaya desde la que le hablan piensan que este gobierno extiende la miseria laboral que el hecho de que se vayan haciendo cosas que se luche contra el fraude que se estabilicen dos mil empleos temporales gracias a la inspección

o impulsando y fomenten con tenacidad un diálogo social aun a pesar de que no todos los agentes están en la misma línea que algunos se ausentan y hablan desde la atalaya y no desde la mesa para ellos todo eso es extender la miseria pues lo siento señor casanova porque los socialistas

opinión seguimos defendiendo que ya es hora de que la mejora de esos datos macroeconómicos vaya acompañada de la recuperación salarial si queremos empezar hablar

lo perdido durante ese tiempo yo creo señor casanova que se lo dije con claridad y usted ha insistido hoy en ello en el pasado pleno

es porque compartíamos que la negociación colectiva nos guste o no es un asunto que implica e incumbe no desde el punto de vista técnico sino sustantivo a los agentes sociales

y a los representantes de la parte empresarial a la patronal y que ambas partes tienen autonomía en el ejercicio de esta materia aunque sí es cierto que no tienen los mismos instrumentos unos y otros y que por tanto son ellos los responsables de desarrollar la negociación colectiva y de conseguir que esa negociación colectiva dé sus frutos

a impulsarla para que las partes logren acuerdos por eso su insistencia permanentemente a que se sienten en torno a una mesa porque es la única forma sentándose en frente los unos de los otros cuando se pueden lograr acuerdos si no se acude a una mesa es imposible llegar a un acuerdo sabe usted y lo ha dicho aquí

una subida general de los salarios no podemos hacerlo sabe que hace falta esa negociación colectiva sabe que hace falta

y nosotros lo que hacemos es apelar y aquel día apelamos a esos agentes para que negocien a todos a la patronal para que no dificulte y no impida la consecución de nuevos acuerdos que permitan una subida de los salarios de los y las trabajadores pero también a los sindicatos y se lo dijimos

se niegan a defender estos intereses de los trabajadores en las correspondientes mesas y que apuestan por una negociación colectiva empresa

señor casanova recuerde que yo en mayo le trasladaba dos cuestiones que decía que para revertir la situación de la pérdida adquisitiva de los trabajadores hacían falta dos cosas una era revertir la reforma laboral en el congreso de los diputados esa reforma que ha desequilibrado la situación de poder entre patronal y sindicatos algo que hoy se ha caído de esa moción por eso creemos que llegamos a un buen acuerdo

imprescindible restablecer la unidad de acción sindical ni lo uno ni lo otro se han producido eso es cierto más bien lo contrario ayer pudimos comprobar también en algunos titulares de prensa lo alejados que están unos sindicatos

bajo mi punto de vista que todos antepusieran los intereses de los trabajadores a los que tienen que proteger frente a los intereses de su propia organización y que utilizaran las herramientas que nos posibilita el marco de relaciones laborales vasco para lograr el objetivo de que en euskadi todo trabajador y toda trabajadora pueda acogerse y esté protegido porque no es algo baladí por un convenio colectivo firmado en esta comunidad autónoma señor casanova usted lo sabe y también lo pusimos en el acuerdo de mayo y hoy se ha vuelto a caer en su moción

tanto la patronal como los sindicatos lo tienen en el país vasco puesto y firmado el diecisiete de enero acuérdese ese acuerdo de estructura que tienen que llenar de contenido

vascos y a las trabajadoras vascas entonces ese es el acuerdo que si llenan de contenido si llegan a acuerdos permitirá tener unas condiciones más justas en salario una mayor estabilidad

pero yo creo sinceramente que hoy eh bildu ha traído este tema aquí para plantear otra cosa otra cosa que le han contado desde un poco más arriba y él decía

que nos íbamos a poner de perfil nosotros en mayo no nos pusimos de perfil otros

otros se pusieron de perfil nosotros no nos pusimos de perfil en mayo

yo no sé si por incomodidad es usted y usted lo sabe usted ha decidido venir unilateralmente otra vez a esta cámara a traer un acuerdo que ya estaba adoptado quitándoles una parte y poniéndola otra cuando

complicidad en aquel momento y nos ha dicho quién cómo y dónde yo no voy a hacer referencia a otros asuntos de la política general me voy a centrar

lo sabe patronal y sindicatos cómo a través del acuerdo dónde en la negociación colectiva no hay otra forma de hacerlo por tanto no nos ponemos de perfil sino que nos mantenemos muy de frente
en aquel acuerdo del mes de mayo otros son los que se están moviendo muchas gracias eskerrik asko castelo anderea euzko abertzaleak gorospe anderea zurea da hitza

jo ez duzun erantzuna horren azterketa txiki bat su interpelación qué intención tiene el gobierno en relación con la proposición aprobada sobre la necesidad de acometer una subida general de los sueldos en la comunidad autónoma ante los descensos sufridos en los últimos años

al gobierno y sus miembros les compete facilitar lugares de encuentro y diálogo permanente donde los titulares de las relaciones laborales puedan llegar a acuerdos el gobierno está favoreciendo impulsando e insistiendo

el gobierno tiene el convencimiento de que hay margen para que los salarios crezcan

realizó un análisis de la situación de los últimos años se basó en los informes del consejo de relaciones laborales datos que usted también utiliza y maneja

planteó en segundo lugar el análisis de la situación actual crecimiento sólido con creación de empleo y con incremento de productividad mayor que el estado

tres realizó previsiones previsiones de recuperación previsiones de necesidad de incremento

cuatro concluyó que se precisa esa subida salarial en base a dos tipos de razones razones de equidad hay que tener en cuenta que la distribución de la renta ha empeorado con la crisis

hay que evitar que la economía vasca dé un paso atrás subir los salarios además de contribuir a mejorar los ingresos de las arcas públicas favorece el consumo y la actividad señor casanova no es una respuesta insuficiente se ponga usted como se ponga es una respuesta objetivamente más que suficiente a su interpretación objetivamente una respuesta de nota

kolektiboaren araberakoa dela efectivamente dependen fundamentalmente de la negociación colectiva que desde años sufre una situación de parálisis que impacta en las subidas salariales

y la reforma laboral han transformado el modelo de relaciones laborales pero la negociación colectiva sigue siendo un asunto que implica a los agentes sociales organizaciones

de las relaciones laborales son los responsables de que la negociación colectiva se materialice y no pueden huir de su responsabilidad

ese es el debate y usted escapa de ese debate o mejor dicho

de ese debate escapa intermitentemente de ese debate y nos vuelve a todos ya lo está viendo no y por ello voy a hacer una mención cronológica

realiza usted solicitudes de comparecencia a los principales agentes sociales constata la paralización de la negociación colectiva pero y le cito todo no es negativo recientemente se ha alcanzado un pacto

que se puede considerar un hito se refiere al acuerdo de estructura de enero del diecisiete a sindicatos y organizaciones empresariales que planteen sus análisis y propuestas le reconozco que era un buen planteamiento y ponía en valor ese pacto histórico

vamos conociendo planteamientos de diferentes agentes que suman propuestas

en representación de ela ni hito ni pacto ni análisis ni aportaciones ni nada no le contesta a usted a nada

formalmente así lo hacía pero usted y yo sabemos que el mensaje era para su grupo parlamentario escuchando lo que escuchaba

solo era su reacción la suya señor casanova usted podría haber reaccionado como en el pleno en el que se debatía la creación del órgano de coordinación interinstitucional de turismo lo recordarán bien

de ocariz y el señor uribe etxebarria creo al entender que no se ajustaba a la justificación que luego vimos que sí se ajustaba usted sin decir ni egun on bajo a esta tribuna salió a esta tribuna y grito qué chapuza qué chapuza qué chapuza

al no ajustarse a su solicitud con esa contundencia no le dio las gracias y poco más mensaje recibido y sumisión cinco de mayo interpelación a la consejera san josé

el gobierno está en un mero papel de observador respuesta de la consejera también de nota revísela revísela para usted insuficiente qué novedad

plantea moción veinticinco de mayo debate en la moción

tenemos una negociación seria y llegamos a un acuerdo muy trabajado como usted lo explica en la página setenta del diario de sesiones y le cito aunque ya se lo han citado pero

hemos tenido que incorporar voluntades hemos llegado a un acuerdo sin ningún tipo de complejos hemos llegado a un buen acuerdo porque existía la posibilidad de llegar a un buen acuerdo podíamos haber optado por el lucimiento y por la confrontación pero hemos entendido que existiendo la posibilidad de un acuerdo bueno es siempre mucho mejor que esa confrontación buen acuerdo frente a confrontación y nos vaticina los titulares de prensa del día siguiente el titular va a ser y usted lo decía así

cuáles fueron los titulares gara

una subida salarial de forma generalizada el grupo noticias el parlamento vasco reclama a las empresas una subida general de sueldos grupo vocento el parlamento defiende una subida de salarios con carácter general incluso expansión

subida de salarios con carácter general lo tenía todo un buen acuerdo unos buenos titulares una buena reacción del gobierno aparentemente e incluso no tenía ningún complejo pero qué le faltaba tres días después

irrelevante el acuerdo en torno a la negociación colectiva alcanzada en el parlamento pnv eh bildu

y vuelta a empezar para usted nuevo periodo de sesiones interpelación respuesta insuficiente moción consecuencia de interpelación hasta hoy

buen acuerdo tirón de orejas sumisión confrontación buen acuerdo tirón de orejas sumisión confrontación

por favor señor casanova háganos un favor a todos bájese de esa montaña rusa tutelada bájese bájese no hemos presentado enmienda a su moción y vamos a votar en contra como

porque es una distorsión de un buen acuerdo vigente y porque es una devaluación de la voluntad negociadora de esta cámara con esta postura consideramos más vivo que nunca el acuerdo de veinticinco de mayo reivindico aquel texto

que persigue el empleo estable y de calidad que impulsa la negociación colectiva desde el pacto del diecisiete de enero y desde la prioridad del ámbito vasco de negociación y que

considera necesario acometer una subida de salarios con carácter general

colectiva reivindico aquel texto que lleva su firma y que consiguió el apoyo del setenta y seis por ciento de esta cámara

reivindico aquel texto a través del cual conseguimos y le cito llegar a un buen acuerdo y mandar un mensaje positivo a la

señor aiartza usted va a hacer aquí dos cosas curiosas

en contra de un párrafo literal pronunciado por el lehendakari en esta cámara va a votar en contra de una propuesta del lehendakari de su propio partido político

la segunda es que en vez de realizar usted hoy una tarea parlamentaria

sobre la práctica parlamentaria del parlamentario iker casanova y ha ido mirando pues bueno todas las comparecencias por lo menos reconozca que hay una labor

cuestión por parte de mi grupo parlamentario y por parte de mi persona y que gracias a eso este debate que a ustedes les incomoda está aquí y como decía el señor damborenea va a seguir estando porque a mí desde mayo no es que me haya pasado nada en particular

el problema es lo que no ha pasado en esta sociedad y lo que no ha pasado en esta sociedad es que se haya cumplido el acuerdo parlamentario y repito

para provocar que pasen cosas y las cosas que ese acuerdo quería provocar que pasaran no han pasado qué es lo que se ha cumplido del acuerdo del siete de mayo se ha derogado la reforma laboral

se ha restaurado la negociación colectiva se ha producido

qué es lo que ha pasado para estar tan satisfechos con un acuerdo que no se ha cumplido yo no cambiaría ni una coma de ese acuerdo

que no se pueda y se deba ir más allá precisamente para trabajar por la materialización de ese acuerdo porque para lo que estamos hoy aquí es para que ese acuerdo se cumpla a ustedes

y su contenido parece ser que les trae al pairo nosotros estamos aquí porque desde mayo las tendencias han sido las mismas y la situación no se ha revertido la señora castelo parece que no me ha escuchado porque dice que no he citado el dato de esta semana no solo lo he citado lo he citado y lo he comentado en el sentido de que no supone una subida salarial real sino que supone una nueva constatación de la progresiva pérdida de poder adquisito de los salarios porque a pesar de subir nominalmente los salarios incluso este año

poder adquisitivo entonces escúcheme un poquitín mejor el acuerdo de mayo era un punto de partida que defendemos es un acuerdo

y es la hora de decir las cosas y llamar las cosas por su nombre solo hay un agente

subida se tiene que dar en las mesas de negociación porque en esas mesas de negociación hay una parte que quiere subir los salarios en los términos que son posibles económicamente no las empresas que van a cerrar no mezclemos cosas es posible subir en la mayoría de las empresas los salarios porque hay beneficios para ellos y solo hay una parte un agente social que no quiere que se suban díganme qué sindicato

no suscribe el acuerdo de mayo díganme qué sindicato es la patronal

dado que el acuerdo de mayo fue insuficiente para mover a la patronal de sus posturas creemos que era necesario dar una continuidad y ahora no ya no es ponernos si me permiten el humor

me parece que aquí hay alguien que no quiere subir los salarios que es lo que hicimos en mayo

del contenido del acuerdo no del formato como criticaron otros sino del contenido

era la patronal y ahora creemos que ya no es necesario entrar en indirectas sino que hay que decirlo de una forma más directa y clara a la patronal

a repetir obviedades el marco es la negociación colectiva pero quien ha bloqueado la negociación colectiva con los instrumentos que le ha dado la reforma laboral del partido popular precisamente para hacerlo

y es ella la que tiene que sentirse emplazada y ustedes no se atreven a llamar a las cosas por su nombre ustedes no se atreven a decir que es la patronal el único agente social que no quiere subir los salarios y se remiten de forma genérica

no es un problema de estrategia sindical ni los convenios firmados en empresa

están recogiendo aumentos del poder adquisitivo de los trabajadores porque los convenios que se están firmando a día de hoy están por debajo de la inflación por tanto no es un problema de que no haya sindicatos que no quieran firmar convenios el problema es que la patronal no quiere firmar convenios justos que repartan

villarreal con quien tengo contacto y además me parece muy bien como con el resto de sindicatos y lo reivindico tengo contacto también con todos los sindicatos como si tuviera que venir a una comparecencia parlamentaria para que yo supiera

ya sé que tienen aquí un papelón tiene el papelón de decirle a la mayoría de la gente de este país que ven como sus salarios están perdiendo poder adquisitivo que este gobierno no se atreve a hacer nada para revertir esta situación

tarea parlamentaria como decía el señor damborenea quién no quiere que le suban el sueldo efectivamente

de que suban el sueldo estamos hablando de quién no quiere que se suba los sueldos a los demás y ese quién

esta no es una cuestión de que queramos que se suban los salarios

cobrar más o tener más dinero y

de que el poder adquisitivo de las y los trabajadores ha disminuido en los últimos años y ha disminuido respecto las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital y ha disminuido las rentas del trabajo

respecto a la riqueza del país y ha disminuido las rentas del trabajo respecto a lo que aumenta el coste de la vida ha ido en aumento esa diferencia

esto no son una necesidad de que se suban los salarios

es una cuestión de reparto de la riqueza es una cuestión también de justicia social

que se crea en el país en estos momentos se está quedando en manos de unos pocos que es la gran patronal y es la que defiende el modelo que permite

nuestras posiciones no son posiciones ingenuas ni posiciones para

en una afirmación así claro seguro todos estamos de acuerdo no lo que estamos diciendo

se han puesto medidas concretas para aumentar esas diferencias

igual que la otra vez nos parece importante señalar que todo este marco

porque alguien quiere que se quede porque alguien quiere que haya una nueva situación en las condiciones de trabajo una nueva situación en las relaciones laborales

es quien es beneficiario de esa nueva situación y ese alguien es la patronal y por lo tanto nosotros aquella vez no nos pusimos de perfil señora castelo

nos parecía absolutamente insuficiente el acuerdo al que se había llegado absolutamente insuficiente

nos abstuvimos porque nos parecía insuficiente por varios aspectos y uno de ellos era precisamente que en el texto aquel se excluía a la patronal de esa responsabilidad sí señora castelo desde luego en nuestra opinión sí se la excluía y solo había que ver la diferencia del resultado final con las iniciativas originales que venían

desde la izquierda y porque además en aquella iniciativa se excluía también la crítica a la reforma laboral de dos mil diez y nosotros

porque las dos reformas laborales son parte de medidas estructurales que han venido siendo aplicadas en los últimos años precisamente para que el resultado sea este

debilidad de la parte trabajadora y un mercado laboral mucho más desequilibrado que el anterior y por lo tanto una mayor posición de fuerza de la patronal y por lo tanto en definitiva una mayor situación de desigualdad y por lo tanto nosotros hoy en nuestra enmienda mantenemos

que en aquella ocasión ampliándolo con medidas concretas claro ampliándolo con medidas concretas porque no nos vamos a mantener no vamos a reproducir exactamente lo mismo que la otra vez

vamos más allá y he explicado algunas de ellas ustedes hacen referencia continuamente y lo hicieron también la otra vez a que este es un asunto de la negociación colectiva exclusivamente

allí en las mesas de negociación colectiva pero es que el núcleo del problema está precisamente en que esa negociación colectiva en estos momentos está viciada

legislativos que hacen que esa negociación no se pueda dar y por lo tanto es labor también de los políticos y de los grupos parlamentarios posicionarnos y no echar balones fuera y decir que se entiendan los patrones con los obreros porque si la relación en una situación normal ya es una situación de desigualdad de poder de fuerza entre los empresarios y los trabajadores en estos momentos

no hay ninguna posibilidad de resolución de este problema del poder adquisitivo y de la pérdida de condiciones de trabajo de las y los trabajadores la actual situación de la negociación colectiva y por lo tanto a nosotros nos parece muy importante mantener estos debates también en los parlamentos y no

a ello y todas las medidas que nosotros hemos propuesto en nuestra enmienda estoy seguro que son compartidas por muchos sindicatos por lo tanto se lo digo una vez más porque ya se lo he tenido que decir muchas veces en esta cámara no pretendemos sustituir a los sindicatos

tener nuestra opinión sobre las cuestiones que afectan al mundo del trabajo y esa enmienda es nuestra opinión sobre esta cuestión porque además

ha sacado los titulares de prensa efectivamente aquellos titulares decían subidas salariales y a nosotros

aquella iniciativa nos parecía también insuficiente porque daba lugar
a un titular engañoso la mayoría de la gente cuando leía aquellos titulares amaitu mesedez

la mayoría de la gente cuando lee aquellos titulares se piensa

porque hay que hacer muchas cosas para que suban los salarios no basta con emplazar a la patronal que no va a subir los salarios por su cuenta y riesgo todas las subidas salariales

muchas gracias señora presidenta bueno al final resulta que esto no era para que se subieran los sueldos sino que era para criticar a confebask

en el último trimestre han subido un uno coma quince por ciento se acordó la subida del siete por ciento del salario mínimo y luego se ha vuelto acordar que en el dos mil

hasta los mil euros es decir sí han ocurrido cosas desde mayo hasta aquí

la subida de salarios o la renta disponible de los trabajadores

han disminuido las renta del trabajo en los últimos claro por el paro o sea por el paro ahora

la renta de los trabajadores la renta disponible yo les propongo algo que sí podemos hacer y si tenemos competencias aquí en el país vasco

para los trabajadores y entonces ya van a tener más dinero disponible porque como ustedes saben algunas personas les suben el sueldo y resulta que se lleva menos dinero porque si pasas de tramo te sacuden bueno

la renta disponible de los trabajadores vascos a nosotros también y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo lo podemos hacer en las juntas generales

y visto el interés que han demostrado en esta materia ambos dos portavoces oiga cuanto antes lo hagamos cuanto antes entre en vigor

zurea da hitza al señor damborenea no le hace falta más tiempo porque todo lo solucionan todo con la bajada de impuestos es una cosa
hablamos de salario bajada de impuestos hablamos de servicios bajada de impuestos en fin cada uno como digo yo

que tenemos un papelón papelón

y me pareció un acuerdo muy bueno por parte del parlamento muy bien recogido muy firme muy claro

a sindicatos y a la ciudadanía en general porque es necesario que los mensajes que mandamos sean claros

ese mensaje que fue tan claro y que fue tan firme y que no fue tan fácil de conseguir hoy queramos dinamitarlo y que lo vayamos a tirar por la borda yo creo que me voy a quedar en la parte positiva pero no le voy a favorecer lo siento mucho pero ya desde que recibo clases en casa

la posibilidad de confrontar usted hoy me ha hablado de si se había hecho algo con la reforma laboral no no se ha hecho nada y a eso podemos emplazarnos porque es para no tirar balones fuera

en el congreso de los diputados entonces será ahí donde nuestros compañeros de ambas formaciones la de todos porque estamos todos representados allí hablemos de cómo volvemos a entregar a los trabajadores a través de los sindicatos instrumentos suficientes para que la negociación colectiva vuelva a estar equilibrada porque ese es realmente uno de los

que a nivel estatal hay un emplazamiento para el mes de enero entre patronal y sindicatos

de esa reunión y es la subida general de salarios quiero decir sabemos que eso está en la agenda es una pena

no pueda estar también fijada ya aquí en el país vasco porque claro no se puede llegar a un acuerdo si no se acude a una mesa en la que se pueda llegar a ese acuerdo entonces no entendemos tampoco al cerrazón de no querer

la mesa de diálogo social porque es un instrumento que ponemos a disposición de los agentes sociales tanto patronal como sindicatos desde nuestro marco de relaciones propia

que no beneficia a los sindicatos sino a quienes representan que son los trabajadores porque hay un acosa que está clara cuando un salario no sube por encima del ipc pierde poder adquisitivo

cuando se congela todavía pierde más y eso es un poco la tónica que llevamos en los últimos dos tres años y les voy a poner un ejemplo les voy a poner un ejemplo de lo que significa también la posición de algunas de los agentes sociales

compartimos pero también tenemos unas agentes sociales que a veces son incapaces de ver

de la limpieza de bizkaia está

sin negociación decayó sin subida salarial ni el catorce ni el dieciséis llevan negociando nueve meses primera oferta de la patronal ningún incremento eliminamos el plus de antigüedad y

ajustamos un tema de horarios lógicamente es rechazado por todas las centrales sindicales que se le sientan en frente

y la nueva propuesta que se ha realizado en esta semana

algunos agentes sociales se están agarrando para justificar su actitud del convenio empresa empresa o que los sindicatos confederales hablan de que consiguen a nivel sectorial es decir

esa oferta no es suficiente pues no será suficiente pero igual es necesaria tres años de congelación salarial tres años de congelación salarial estamos jugando

ahí por tanto yo creo y por ser coherente

hoy lo que va a hacer es decir que rechazamos la reforma laboral que instamos a derogar las normas contenidas en la misma que han devaluado y precarizado las condiciones del empleo

y que contribuya a recuperar derechos para las personas trabajadores y crear empleo estable y de calidad que el parlamento vasco y los socialistas consideramos que la situación actual

acometer en el marco de la negociación colectiva le pese a quien le pese

y el parlamento vasco y los socialistas vascos consideramos que el acuerdo interprofesional sobre la estructura negociación colectiva

para el desbloqueo de la negociación colectiva por lo que insta a que se desarrolle y dote de contenido para reactivar la firma de convenios y desde la prioridad del ámbito vasco de negociación avanzar hacia un marco de relaciones laborales más justas en términos amaitzen joan de salarios estabilidad y calidad en el empleo termino señora presidenta este es el acuerdo de mayo

es en el que hoy se va a mantener con su voto el partido socialista

señor hernández un par de apuntes nada más usted ya consideraba

el consejero azpiazu el acuerdo de veinticinco de mayo su texto su

incidía en dos puntos de cinco hacia el gobierno vasco a mí parecer ya totalmente desenfocada bueno la enmienda

de esta moción es de nota ya esta es de nota esta es de nota siete de ocho

un pequeño manifiesto siete de ocho para el gobierno vasco se ha cargado el concepto de titulares de las relaciones laborales se ha cargado usted de un plumazo con esta enmienda a los sindicatos sus funciones sus competencias sus aportaciones su esencia

del señor sordo se lo preguntaré señor casanova eskerrik asko eskerrik asko

en este trabajo de investigación sobre usted es usted

un caso de todas maneras apasionante de estudio papelón el suyo papelón el suyo

la señora otamendi el otro día en la comparecencia sobre siniestralidad laboral simplemente pregúnteselo

ha calificado a este grupo parlamentario de escudero de la patronal mire señor este grupo parlamentario como el lehendakari como el gobierno solo al servicio de la sociedad vasca comprometiendo su palabra en ello y así nos comprometimos con aquel acuerdo de veinticinco de mayo usted al servicio de quién está yo he comprometido mi palabra y mi firma en ese acuerdo

la mía ahí todavía está cuál es el valor de su palabra del veinticinco de mayo hasta el tirón de orejas del treinta de mayo del veinticinco de mayo hasta hoy cuatro días cuatro meses

nosotros entendemos el cumplimiento de nuestra palabra

siendo constantes como en ese acuerdo constantes en nuestros compromisos en la defensa de los acuerdos que firmamos

siendo coherentes son ustedes coherentes nos dan lecciones sobre o pretenden dárnoslas sobre incrementos salariales y al mismo tiempo nos presentan una enmienda

cómo me explica esta enmienda ah ah que ustedes no explican las enmiendas no las defiendes no no

una reducción un impacto una reducción de

que supone esto es una propuesta de reducción de las retribuciones de funcionarios y de personal laboral del departamento de seguridad no son trabajadoras y trabajadores

comprometidos no siendo superficiales no buscando que parezca que es sino buscando que sea no buscando como usted

del día después o no sé o ese azucarillo sea quien sea el que se lo da por cierto últimamente le han dado más tirones de orejas que azucarillos se lo tiene que mirar y siendo responsables

siendo responsables reivindicando lo pactado constantes coherentes comprometidas y comprometidos responsables al servicio de la palabra dada a nuestra ciudadanía como nuestro gobierno y sí me gustaría terminar con un planteamiento que el otro día lo puso encima

gorospe sinceramente creo que es algo básico a la par que tremendamente positivo para la mejora de nuestro trabajo aquí

decía la señora gorospe pues algo así como el parlamento insta al parlamento y sobre todo a sus grupos parlamentarios a que respeten los acuerdos adoptados y no estén constantemente planteándolo estos mismos debate

defendatzeko gracias señora presidenta

hoy traemos a este parlamento nuevamente un debate en relación a la

de configurar un sistema justo y configurar un sistema justo de protección social en la percepción de ayudas sociales es garantizar sin duda que las ayudas lleguen a aquellas personas que realmente lo necesitan y entendemos

el colectivo de autónomos que tiene especiales dificultades para acceder al derecho a la renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda por lo tanto desde el grupo popular consideramos que el criterio

pivotar las situaciones de necesidad a las que van destinadas las ayudas sociales la cobertura de estas situaciones

ideas fundamentales de las que habla el partido popular cuando hablamos de un sistema justo de ayudas sociales por una parte consideramos que es necesario que el gobierno vasco ya de una vez por todas arbitre los mecanismos necesarios

evitar situaciones abusivas irregulares y de fraude que se dan en el sistema de protección social la semana pasada conocimos un episodio

fraudulenta para percibir ayudas sociales con la falsificación de numerosos documentos y en ese sentido también se detuvo a un número importante

que falsificaban documentos para la percepción de ayudas sociales se detuvo en concreto a ciento ochenta y seis personas y personas además que recibían

tenían fijada su residencia en países como holanda italia grecia emiratos y pakistán por lo tanto creo que al hacer una mención a este episodio concreto la pregunta es obvia y es reiterativa en relación a la pregunta que hemos formulado en relación a los controles

la renta de garantía de ingresos por parte de lanbide cuando hay personas que reciben la renta de garantía de ingresos que no viven en el país vasco y están recibiendo esta ayuda viviendo y residiendo en otros países como en este caso hemos conocido en pakistán emiratos árabes grecia italia y demás

estas ayudas que incluso estaban combatiendo en otros países y también que incluso recibían

lanzamos otra vez desde el partido popular el mensaje y solicitamos al gobierno vasco que ya sin demora sin ninguna dilación aborde la reforma

realmente lo necesitan y que se eviten estas situaciones abusivas de fraude e irregulares horrexegatik berriro eskatzen dugu gobernuak gehiegikeriak

ez emateko eta sistema justu bat bideratzeko pero a la vez consideramos y eso es lo que motiva la iniciativa que hoy presentamos que el sistema si tiene que ser justo también tiene que garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que tienen especiales dificultades para acceder a la rgi que es de justicia que estén dentro del sistema cuando este grupo

de ley de modificación de la normativa vigente de la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social modificaba un artículo específico de la ley vigente en relación a que no se compute

fuera a colectivos que tenían que estar dentro del sistema hoy como decía

otros colectivos que también hemos conocido que tienen especiales dificultades para acceder a un derecho que tienen como son los autónomos el otro día

una iniciativa en relación a colectivos que tienen especiales dificultades como son los pensionistas que complementan sus pensiones con la renta de garantía de ingresos y en el marco de esa campaña que se vaya a realizar por parte del gobierno una vez

al mandato de esta cámara de que dicha modificación el proyecto de ley se pueda remitir en el primer trimestre del dos mil dieciocho décimos que en el grupo popular que también hay que hacer un especial hincapié

campaña específica en relación al colectivo de autónomos con el objetivo de que conozcan y tengan la información necesaria para acceder a

por lo tanto traemos hoy esta iniciativa la traemos también a raíz de una resolución

del ararteko sobre el tratamiento de la actual normativa

a este colectivo y situación además que había sido planteada por el propio colectivo de autónomos horrela kasu honetan

nuevamente de que el gobierno vasco tiene que garantizar la accesibilidad

con especiales dificultades como son los autónomos en dicha resolución del ararteko se hace especial referencia a los problemas que tienen los autónomos de percepción de la rgi cuando se produce un descenso

a cesar en la actividad por una merma en los ingresos de la actividad que estaban desarrollando a la hora de la valoración de la cuenta de resultados

se valoran los resultados previos a la baja de los autónomos y si es positiva

que es algo que hay que subsanar de nuevo hasta que transcurra un año cuando un trabajador de autónomo lleva más de un año percibiendo

que son bajos por la merma de la actividad de su actividad como autónomo

se considera que no está destinando la prestación a la finalidad para la que ha sido concedida se realiza la correspondiente comunicación por parte de lanbide

se suspende la prestación porque se considera que no se está destinando

dicha financiación de la rgi a la cobertura de las necesidades básicas se aplica por tanto por analogía a los autónomos que cesan esa actividad el articulo veintiocho

para la garantía de ingresos y la inclusión social de extinción de la rgi cuando se rechace en una ocasión sin causa justificada

del nivel de ingresos lo cual consideramos que no es procedente tal y como ha quedado

antes de hacer referencia por lo tanto creemos que con esta iniciativa hacemos hincapié en un colectivo que tiene dificultades para

de autónomos y por lo tanto hay que facilitar a este colectivo

a la rgi nosotros consideramos que ese sentido hay que hacer una rgi accesible para aquellos que la necesitan

abusos eso es sin duda legitimar y dar credibilidad al sistema de protección social y en ese sentido creemos que consideramos aparte de que el gobierno traiga ya

de la modificación de la normativa vigente en relación a la rgi también

pongan en marcha medidas efectivas para que lanbide realmente funcione

de las ayudas sociales se subsane las deficiencias que actualmente están detectadas en lanbide tanto en el ámbito de la gestión como en el ámbito

nosotros por lo tanto solicitábamos en nuestra iniciativa original una campaña específica en relación al colectivo de autónomo y bueno tengo que decir que

en esta cámara en relación a la realización de esta campaña se va a realizar más específicamente en el marco de la campaña

una vez tramitadas las modificaciones pendientes de la ley para

de dos mil ocho se produzca en el marco de esa campaña

necesaria para que realmente el colectivo de autónomos no tenga dificultades a la hora de materializar su derecho al acceso a la renta de garantía de ingresos y por lo tanto también

en un lenguaje claro las condiciones aplicables a este colectivo a la hora de tramitar los criterios de la rgi todo ello en un formato accesible quiero decir que

en esta cámara recientemente en relación a otros colectivos como he hecho anteriormente referencia a los pensionista que complementan sus pensiones bajas

pues esperemos que este acuerdo pueda ver la luz

pronto en el marco de las modificaciones que están previstas

porque yo no he venido a hablar de otra cosa si no de la iniciativa que tenemos sobre la mesa en euskadi hay datos por ejemplo de enero de dos mil diecisiete que hablan de más de diecisiete mil personas que trabajan como autónomas

en euskadi también hay muchas personas perceptoras de prestaciones sociales o no que están perdidas en cuanto al conocimiento de sus derechos y las vías y posibilidades para ejercerlo

sobre el derecho a la información de todas en especial cuando se trata de derechos sociales fundamentales para la subsistencia podríamos traer otras muchas iniciativas como esta o como la de la semana pasada porque esto afecta a las personas pensionistas afecta a las personas que desempeñan su trabajo como autónomas y en general

que en algún momento sea susceptible de poder ejercer el derecho

de que a la hora de abordar campañas informativas las tengamos a todas en cuenta debemos ser capaces en este momento de oportunidad de construir un sistema de garantía de ingresos mejor un sistema de garantía de ingresos abierto informado y que informe

administrativas o burocráticas dicho esto y

y dado que las personas autónomas no son desde luego menos que ningún otro colectivo sí es verdad que hay que reconocer que tienen una situación específica y especialmente compleja que ha de ser respondida cuanto menos con información específica como pasa con los pensionistas o como puede pasar con las personas sin hogar con las mujeres ya lo decía hace dos semanas y lo vuelvo a repetir hoy

aprobada en el mes de mayo en la que se acordó realizar una campaña

haciendo un enfoque que nos permita desde luego adaptar las campañas y las comunicaciones que se hacen a la población a los intereses y a las necesidades es importante señalar que aunque no existe un perfil único de personas preceptoras de prestaciones sociales

dentro de las personas perceptoras en concreto las personas que desempeñan su labor como autónomas tienen características particularmente complejas paso a señalar algunas

en la web de lanbide no se menciona de forma clara que quien tenga un pequeño negocio trabaje a tiempos para dar formación para prestar algún servicio específico

que tienen derecho la poca información que hay es confusa

hemos encontrado que solo se las nombra en el documento de criterios de lanbide por lo menos que hayamos sido capaces de ver la información que contiene tanto la ley en general

así como la información que contiene el capítulo cinco del documento de criterios resulta compleja de abordar la forma de adoptar determinadas prácticas en el día a día de lanbide también resulta complejo porque como es compleja abordar lo normativa eso implica que las personas que van a tramitar la renta de garantía de ingresos no sepan a que tienen o no tiene derecho pero también implica

de hacer el trámite para otras personas no siempre tengan criterios homogéneos que ayuden a garantizar algo tan importante como un derecho subjetivo pero voy

yo no he venido aquí a hablar de otra cosa pero además porque nosotras sí llevamos tiempo reclamando que la rgi

ser más flexible para poder llegar a más personas en ese sentido en concreto con las personas autónomas hay trabas que yo creo que tenemos que ser conscientes por ejemplo se les obliga a presentar una declaración fiscal una declaración jurada de ingresos mensuales para acreditar estos ingresos se establece en caso de pérdidas del negocio de actividad profesional

cuestión que resulta cuanto menos bueno injusta si lo comparamos con otras

en el caso de ser una ciudadana que trabaja por cuenta ajena es complicado pero ya por cuenta propia

además las personas autónomas siguen encontrando dificultades que tienen que ver desde luego con cuestiones que ya se han abordado sobradamente en esta cámara como la ineficacia a la hora de

en la seguridad social las declaraciones de ingresos que hacen que se generen de manera sistemática pagos indebidos y eso es algo que desde luego está encima de la mesa del debate y está en proceso de mejora todo esto resulta complicado como resulta complicado también que se establezca por ejemplo un suelo máximo de tiempo de crisis

consensuamos entre todos los grupos que tenemos representación en esta cámara que las personas autónomas tienen una situación específica unas condiciones específicas y necesitan información específica hasta ahí

tenemos todo un proceso por delante que es la reforma de lanbide donde tendremos que abordar un montón de cosas y la reforma de la normativa donde tenemos que abordar un montón de cosas me parece cuanto menos desagradable que venga usted aquí con un acuerdo sobre la mesa que es lo que hemos pactado a hablar de otras cuestiones que desde luego

un acuerdo en ningún caso nosotras consideramos importante que hay que continuar trabajando para dotar

desarrollar cuantas campañas informativas permitan a la ciudadanía un mayor y mejor ejercicio de derechos porque una sociedad solidaria como la nuestra ha de garantizar la protección y el bienestar de todas las ciudadanas y ciudadanos teniendo en cuenta por supuesto siempre aquellas que puedan generar mayor vulnerabilidad bien por sus condiciones por la falta de información a partir de aquí pasos adelante pasos atrás ni medio en ningún caso no se nos olvide todas nosotras también ustedes desde el partido popular tenemos la obligación de proteger y prestigiar un derecho que hemos construido entre todas para ello campañas informativas no hay duda para ello avance no hay duda para ello posicionarnos y desde luego señora garrido ser responsables

los discursos que hacemos y poner por delante de todas las cosas la protección de las personas que es de lo que hoy estamos hablando no

gaurko eztabaida prestazioen ingurukoa da ez da laguntza sozialen ingurukoa es un debate sobre derechos sobre prestaciones sociales y no sobre ayudas sociales y desde luego muchas de las cosas que usted ha dicho

tienen poquito que ver con la justicia social con la que según usted debe pivotar este sistema de la renta de garantía de ingresos

muchas gracias presidenta debatimos hoy la proposición de ley referente a la realización de una campaña informativa

de solicitar la renta de garantía de ingresos por el colectivo de autónomos este debate no es nuevo dentro de este periodo de sesiones hemos debatido

de realizar campañas informativas en relación con los perceptores de la renta de garantía de ingresos en diferentes enfoques

estamos convencidos de que nuestra responsabilidad no es solo garantizar más derechos sino

en realidad y para eso creo que hace falta llegar a quienes desconocen y tienen esos derechos tan es así que por citar

que cumplen los requisitos que pueden reclamar al gobierno un techo

bajo el que vivir por eso después de oír

garrido y a pesar del acuerdo unánime que hoy hemos alcanzado nos lleva a pensar a los socialistas que lo que parece

la propuesta que debatimos hoy aquí no es su contenido no es el interés del colectivo al que alude sino el interés del grupo proponente para reproducir un discurso restrictivo de derechos en el que se ha empeñado cuando el empeño del resto de los grupos parlamentarios de esta cámara es fortalecer el sistema de protección porque de nuevo y ya lo sospechábamos ha sacado a colación la línea argumental de que la renta de garantía de ingresos no llega a colectivos que ustedes dicen de aquí porque

otra vez confrontar a personas con necesidades en vez de ir a eliminar esas necesidades

denunciamos y que tiene su origen en la falsificación de documentos cuya vigilancia y control

los socialistas aprovechamos para felicitar a la policía nacional por esta operación así como al conjunto de las fuerzas policiales que combaten a quienes se valen

los socialistas felicitamos también a quienes día a día trabajan en lanbide para garantizar que las ayudas les lleguen a quienes lo requieren y cumplen los requisitos y los socialistas nos felicitamos y estamos satisfechos de forma parte de una sociedad a la que

según donde hayan nacido sino porque hayan tomado la libre decisión de ser parte de euskadi

sea en prestaciones sociales o sea por no pagar impuestos y reiteramos nuestro rechazo a las posiciones excluyentes a los discursos que segregan

religión o identidad nacional pero como sobre todo tenemos un profundo respeto a quienes hoy

la economía mejora como respetamos el esfuerzo y las dificultades de tantos autónomos vamos a recordar de dónde venimos para que dibujemos

en el pleno del once de mayo de dos mil diecisiete se debatió ya

sobre la necesidad de prestigiar y dar a conocer la prestación y el derecho subjetivo de la renta de garantía de ingresos y dentro de la enmienda a la totalidad firmada por el grupo nacionalistas

con el voto en contra del partido popular y la abstención de

se acordó que el parlamento vasco ya instara al gobierno vasco a que una vez alcanzado el amplio consenso para consolidar y mejorar el sistema de garantía de ingresos

se realizará una campaña de comunicación que dé a conocer esas modificaciones también en el pleno del treinta

otra proposición no de ley relativa a la propuesta en marcha de una campaña de comunicación

más bajas volvimos a hablar de este tema dentro de la misma se llegó a aun enmienda

y contó con el voto a favor del partido popular donde se instaba por el parlamento vasco al gobierno vasco a realizar una campaña de información necesaria para dar a conocer

que las personas pensionistas tienen a completar sus pensiones más bajas por supuesto se consideró abordar esta campaña informativa dentro de la reforma de la renta de garantía de ingresos y una vez concluida y todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en que es importante llevar a cabo esta campaña comunicativa donde se informará a los ciudadanos de los aspectos más relevantes de la reforma así como lo referente al complemento por la renta de garantía de ingresos

indicados y además estamos de acuerdo en que es importante conseguir el máximo consenso en esa reforma del sistema de garantía de ingresos es importante que las personas puedan vivir con dignidad cuando se interrumpe

por cuenta ajena o autónomos y cuando sus salarios aun trabajando son bajos o cuando se jubilan hay que recordar

han remodelado su sistema de garantía de ingresos al objeto de hacer fácilmente compatible la percepción de un bajo salario

al empleo de las personas perceptoras de renta de garantía de ingresos y dar una respuesta

pobres garantizando así un nivel de bienestar mínimos a la población trabajadora en esta ocasión hemos llegado a un acuerdo en los mismos términos respecto a los trabajadores autónomos perceptores de la renta de garantía de ingresos lanbide también asume el reconocimiento de la renta de garantía de ingresos en el régimen de autónomos en los términos indicados

en el propio informe diagnóstico del sistema de garantía de ingresos

en lo referente a las rentas de trabajo en la determinación de los casos en los que la interrupción de la actividad es por cuenta propia

de una renta de garantía de ingresos sin que se considere que se ha producido un abandono voluntario de la actividad económica laboral hay que esperar a conocer

dentro de la reforma para luego llegar a realizar esa campaña una vez concluida la misma

también se pone de manifiesto la importancia que tiene en determinados ámbitos profesionales en la actividad por cuenta propia que en fases iniciales

temporal puede producir un ingreso un nivel de ingresos limitado

constituir un factor que puede contribuir al mantenimiento de ciertos trabajos independientes o autónomos es por tanto por lo que consideramos que es importante al enmienda transaccional que hoy hemos firmado de todos los grupos parlamentarios de esta cámara para llevar a cabo esa campaña informativa también una vez que se concluya toda la reforma

para que se informe a esas personas trabajadoras autónomas

bajos ingresos mediante la renta de garantía de ingresos y también

especifique en un lenguaje claro todas las condiciones

autónomos y que además se realice de una forma accesible para toda la población es importante que los autónomos conozcan esta posibilidad y el procedimiento a seguir para que puedan hacer uso de ese derecho en caso de necesidad y a través

hemos firmado se completa también con este colectivo que se vaya a realizar esa campaña informativa que una vez concluida la reforma pues tiene mucha importancia nada más y muchas gracias

yo creo que a todos ustedes les suena el debate verdad porque hemos perdido ya la cuenta de las distintas campañas informativas que se le han pedido al gobierno vasco

para dar a conocer la renta de garantía de ingresos para colectivos concretos el día de hoy la campaña informativa es para trabajadores y trabajadoras autónomas hoy no es el día para hablar o interpelar al gobierno o para hablar de reformas de lanbide o para porque

siempre y cuando se presente una iniciativa al respecto eusko jaurlaritzari informazio kanpaina zehatza eskatzen zaio langile autonomoentzat oinarrizko ekimenean

informazio ezagatik es cierto que la iniciativa original del partido popular no establece el plazo en el que se ha de poner en marcha la campaña de información entre los autónomos

poner en marcha la campaña solicitada en este momento en el que nos hayamos inmersos en un proceso de modificación normativa nos parece fuera de lugar

y supondría además una mala gestión de los recursos públicos como hemos dicho en las múltiples ocasiones que hemos debatido sobre campañas de publicidad para colectivos concretos el grupo nacionalistas vascos no se niega a que dichas campañas se puedan realizar

para que sea más eficaz y por responsabilidad en la gestión de los recursos públicos bestalde garrantzitsua iruditzen zaigu gaia ondo kokatzea

okupatu egiten da hemos alcanzado una enmienda transaccional todos los grupos de la cámara porque estamos de acuerdo en que en la campaña de publicidad que se realice una vez aprobada la modificación de la ley para la garantía de ingresos e inclusión social

para el colectivo de trabajadores y trabajadoras autónomas colectivo que también a nuestro juicio necesita especial protección dada su situación de vulnerabilidad

mientras se aprueba dicha modificación pedimos a lanbide que publique en lenguaje sencillo y en su página web las condiciones aplicables a las personas trabajadoras autónomas

los criterios de tramitación de lanbide presentados en este parlamento y debidamente publicados

acordamos que dicha información conste en un formatu accesible para toda la población en la misma

en otras ocasiones y que el gobierno comparte y está tomando medidas al respecto por lo tanto para finalizar simplemente poner en valor el acuerdo que se va a aprobar por unanimidad referente a la publicación

las características que pueda tener el colectivo de personas autónomas para poder acceder a la rgi y al pcv besterik ez mila esker

gracias señora presidenta bueno brevemente porque yo creo que también el acuerdo es claro en relación a la realización de actuaciones específicas en el marco de la campaña para facilitar el acceso a la rgi a colectivos

pero sí que me gustaría matizar o dejar claras algunas cuestiones yo creo que una cosa no quita la otra y cuando hablamos de que el sistema sea justo y que

significa que las ayudas lleguen a las personas que realmente lo necesitan estamos hablando de que lleguen a las personas con especiales dificultades el otro día lo hicimos con los

con la renta de garantía de ingresos hoy este grupo ha traído una iniciativa en relación a los autónomos este grupo también ha planteado debates en concreto

a lo que he hecho referencia en mi primera intervención no se compute patrimonios des escaso valor junto con la vivienda habitual a la hora de la percepción de la rgi

y si recientemente ha habido una noticia que ha causado una preocupación este grupo la trae a colación indudablemente sobre esta materia no es exactamente el objetivo de la iniciativa para eso hemos presentado múltiples iniciativas a lo largo de todos estos años este grupo

hemos pedido la comparecencia de la señora consejera en comisión para que nos explique todos los detalles en relación a la desarticulación de esta red a los controles es que es nuestra obligación como oposición o acaso ustedes están de acuerdo especialmente

de que se esté cobrando por parte

me da igual cualquier nacionalidad y me da igual cualquier persona que pueda estar recibiendo una ayuda de estas características y no esté residiendo

personalizado para la inserción laboral o acaso no coincidimos en que eso daña el prestigio del sistema daña la legítima del sistema yo creo que

eso es decir claramente que si los controles y lanbide no funciona en el control de las ayudas sociales porque se producen estas situaciones tendrá que arbitrar los mecanismos necesarios para que el sistema

el sistema y garantizar la sostenibilidad y el futuro del sistema yo también señora sánchez me alegro

felicitamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y en concreto a la policía nacional por la desarticulación de esta red

la existencia de un fraude en relación a las ayudas sociales por eso efectivamente defendemos su presencia en el país vasco

para la ciudadanía vasca porque realizan labores muy importantes y muy relevantes como es la desarticulación de este tipo de redes y no pedimos

del país vasco pero yo creo que ante situaciones de este calibre pues no podemos mirar para otro lado y los grupos con representación en esta cámara y que representamos a los ciudadanos vascos

desde luego el derecho a la rgi es un derecho subjetivo señora kortajarena pero no porque lo determine

y lo determina con unos requisitos de acceso determinados y lo que tiene que hacer lanbide es verificar que se cumplen esos requisitos de acceso a la hora de dar esta prestación y

pero también lanbide tiene que verificar que sigue cumpliendo esos requisitos

y también lanbide tendrá que dar una oportunidad a esas personas o todos queremos que se aboque a esas personas a

del sistema y no creo sinceramente que sea un objetivo que compartan ustedes si hablamos con

y no solo mejora si no subsanar aquellas deficiencias que tiene el sistema que consideramos que son múltiples hoy el debate de los autónomos

exhaustivo repaso de las dificultades especiales dificultades que tiene este colectivo para acceder a la rgi en relación a la poca información que existe

a esta cuestión en el conocimiento a la información del acceso a la rgi en el conocimiento de que se tiene derecho a la rgi no se da la información adecuada no existen criterios

de garantizar la accesibilidad a un colectivo que tiene especiales dificultades pero

es que el sistema sea justo y eso conlleva también otras actuaciones por parte del gobierno vasco por parte de lanbide

se pongan en marcha para desde luego subsanar las deficiencias que a nuestro juicio

se nos puso a caldo por querer implantar la huella digital y luego al final el gobierno pues es una herramienta que va a utilizar precisamente

eskerrik asko mahaiburu andrea vamos por partes tres cosas muy breves la primera compañeras digo compañeras porque somos cinco mujeres hablamos

también conscientes del uso del lenguaje cuando hablamos de ayudas le quitamos a la garantía de ingresos su carácter de derecho así lo establece la ley

utilizarlo por lo menos en nuestra opinión señora garrido por supuesto que no estamos de acuerdo con el fraude pero me parece un tanto hipócrita que un partido imputado por corrupción

por una parte de las cosas porque eso también es mirar de una manera parcial yo insisto nosotras consideramos que necesitamos un sistema justo coincido con la señora kortajarena en que nuestros conceptos de justicia son bastante distantes

impecable con la gestión de los recursos públicos de todas las personas pero también tenemos que ser impecables en la gestión del papel público que jugamos como representantes de la ciudadanía y en ese sentido también tenemos que considerar el peligro

hagamos criminalización activa de la pobreza en eso tampoco

yo me quiero quedar porque tenemos capacidad de ver las cosas medio llenas o medio vacías

con la capacidad que hemos tenido de poner en el centro un acuerdo para unas cosas concretas no estamos de acuerdo tenemos tiempo oportunidad posibilidad de discutir largo espero que lo hagamos todas desde la responsabilidad hoy ponemos encima de la mesa dotar esta campaña de contenidos hacer esta campaña enfocar una campaña informativa a necesidades específicas evaluar estas campañas también es necesario no ha podido salir en el acuerdo espero que podamos seguir de ello y desde luego poner a las personas en el centro tenemos que ser capaces de manejar esto desde otro lugar señora garrido porque si en esto

perdemos todas señora garrido perdemos todas besterik ez mila esker eskerrik asko guanche andrea

pues el inconveniente señora garrido está en que se desenfoca el debate

todos estos meses de comparecencias han demostrado

que el fraude y que hay otros sistemas que tienen un fraude infinitamente mayor

y entonces lo que ustedes hacen es tergiversar esa realidad ustedes hacen campañas orquestadas basadas

en un fraude que se ha demostrado que es inexistente y si no comparemos noticias de la semana pasada

que se dieron esa misma semana verdad las conoce usted ciento ochenta y pico millónes

con lo cual pues bueno vayamos a nuestro grupo desde luego le preocupa usted nos hace una pregunta

usted me ha oído decir millónes de veces que cualquier elemento que venga a permitir que el sistema esté mejor controlado lo apoyamos porque lo legitima lo hemos dicho mil veces no se haga usted la sorprendida porque hemos repetido

una y otra vez lo hemos repetido una y otra vez pero lo mismo que nos preocupa eso incluso más

el coste social señora garrido de las cincuenta y nueve mil personas que en este momento

pensionistas personas que están en calle personas que sufren violencias machistas esas todas personas están sufriendo situaciones de grave exclusión

y que quedan fuera de un sistema que todos ustedes y todas ustedes dicen que es el mejor con diferencia ese coste social es el que a nosotras nos preocupa y es un coste social infinitamente mayor

y ese es el problema de los discursos que como hoy usted ha venido hacer aquí

o sea que tampoco transgiversemos las cosas

como todos los grupos hemos puesto de manifiesto un tema concreto que era

informativa de la que hemos debatido en otras ocasiones en otros aspectos respecto del colectivo de autónomos para que

para que conozcan en más profundidad los derechos que tienen para poder recibir la renta de garantía de ingresos pero ustedes siguen intentando desviar siempre el discurso al tema del fraude

que el volumen del fraude es mínimo pero siguen queriendo poner siempre solo el foco de atención tengamos el debate que tengamos aquí

para dirigir la reforma en el ámbito

solo y exclusivamente teledirigir y desviar otra vez el discurso hacia esa línea del fraude y eso no es hay muchos comparecientes ahora estamos viendo cómo van viniendo y comparecen en el parlamento vasco distintos comparecientes

que hay que poner en valor las bonanzas de nuestro sistema de garantía de ingresos que tiene muchas cosas buenas y es un sistema bueno y mucho mejor

de españa y desde luego también en relación con otros países de europa y que es una falsedad y es un error poner el foco de atención

que es lo que siguen haciendo ustedes continuamente

y es una forma de distorsionar la realidad que no favorece en absoluto y que la ciudadanía cada vez que la percibe lo que se está dando es una falsedad de la situación y es un error lo que hay que intentar es poner todos nuestros esfuerzos

el sistema de protección de garantía de ingresos luchar contra el fraude por supuesto todos los grupos parlamentarios

pero no poner solamente el foco de atención siempre en el mismo punto porque los focos y las luces son mucho más amplias y ustedes solo enfocan siempre a ese punto

a trabajar todos juntos de verdad en ese consenso amplio del que hablamos continuamente para conseguir precisamente eso tener mucho mejor sistema de protección de garantía de ingresos que el que tenemos ahora en eso

llevando todos los esfuerzos todos los grupos parlamentarios de esta cámara menos el suyo de momento que sigue intentando poner siempre ese foco de atención

la más mínima posibilidad otra vez me voy al mismo sitio de siempre y es muy cansino es muy cansino

que eso no es así y que hoy veníamos a hablar de otra cosa que es la campaña informativa sí de la campaña informativa que se tiene que creemos que es positivo realizar cuando

de diferentes aspectos del derecho subjetivo a la renta de garantía de ingresos también para los trabajadores autónomos que no conocen en muchos casos ese derecho y que es bueno que se la incluya de esa campaña informativa como también se ha metido también para que lo conozcan el complemento a los pensionistas de pensiones más bajas etcétera ese era el objetivo de hoy y desde luego por eso me alegro y estoy satisfecha de que hemos llegado una vez más a un consenso amplio para realizar esa campaña los distintos grupos políticos y con eso me quedo porque es con lo que hay que quedarse con seguir trabajando para seguir mejorando realizare esa campaña que es lo que veníamos a hablar
hoy aquí y seguir avanzando en mejorar ese sistema de protección de garantía de ingresos vasco nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea arregi andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea mire señora garrido es especialista en enredar los debates había unanimidad respecto a la iniciativa original y es usted especialista en enredar absolutamente todo

que diga que el sistema no es justo no se lo voy a admitir y además la iniciativa no

ni una sola vez en su iniciativa ni en la justificación ni en nada la palabra justo que se va a hablar de un sistema justo el sistema es justo

estamos todos y todas inmersos en un proceso de mejora tanto de la ley para la garantía de ingresos y la inclusión social como de la gestión de lanbide si quiere hablar de controles de fraude que tanto le gusta de la labor de lanbide si es buena si es mala

para conocer todas las iniciativas que puede presentar al respecto pero cuando menos me parece poco elegante por no decirle algún otro calificativo

concreta que habla sobre una campaña de publicidad para los autónomos y hablar absolutamente de todo

echando porquería sobre todo el sistema que no creo que ayuda

crear ese acuerdo que creo que buscamos todos los grupos por lo menos desde luego este sí para poder realizar

modificación pausada consensuada para la mejora de la ley que creo que en eso estamos todos y todas de acuerdo el sistema de protección que tenemos es bueno y le insisto es justo potente y por supuesto que mejorable y en eso estamos

actuemos de forma responsable pausada y avancemos pero no incendiando aquí debates y aprovechando

del fraude respecto al tema mire ya que tanto le gusta el fraude a mí me gustaría saber de quién es responsabilidad conocer

el que unos documentos sean falsos o no porque no creo que esa responsabilidad también

trabajadores y trabajadoras de lanbide estoy hablando yo señora garrido su turno ya ha pasado respecto al tema de utilizar el sistema como arma arrojadiza como le decía la señora guanche que no facilita ni favorece en absoluto lo que todos y todas estamos buscando que es tener un sistema bueno y una protección para las personas

reflejan la voluntad de la ciudadanía aunque a algunas no nos gusten y entendemos que al gobierno le corresponde acatar esa voluntad ciudadana y sin embargo

no se está produciendo dos resoluciones ha habido sobre este tema que ya han sido incumplidas por el gobierno de ahí que nos hayamos visto obligados a presentar una tercera

adostasun batera ez iristeko por qué esta obstinación del gobierno

un colectivo que está desempeñando satisfactoriamente su trabajo un colectivo que desarrolla un servicio esencial para la seguridad del país y de la ciudadanía

y un colectivo que tiene unas reivindicaciones justas

que han perdido la antigüedad algunas personas hasta veinte años de antigüedad por la inoperancia de este gobierno que han perdido hasta el plus de transporte que tenían

obliga a pagar hasta doscientos euros de su bolsillo para poder trasladarse hasta el puesto de trabajo y que tiene peticiones tan elementales como descansar un día y medio entre turnos de trabajo

a dos coma siete por qué entonces hace razón del gobierno

esanez begiratu zer gertatzen zaion protestatzera ausartzen denari el objetivo de este gobierno como digo parece ser el de dar un escarmiento dar un escarmiento en primer lugar a los trabajadores y trabajadoras públicas diciéndoles mirad lo que os espera si os movéis vuestras condiciones son mejores

como les está esperando ya en la sanidad en la seguridad y en otros muchos ámbitos y por otro lado dar un escarmiento

subcontratados que se atrevan a protestar y en esa misión de dar un escarmiento se han juntado hasta tres departamentos del gobierno en primer lugar el departamento

obstaculizando cualquier mejora en el pliego de condiciones de la contratación de este servicio en segundo lugar el departamento de gobernanza prohibiendo e impidiendo que el departamento de seguridad pueda mediar y pueda entrar en la negociación entre trabajadoras y empresas y en tercer lugar el departamento de trabajo que en un procedimiento vergonzoso ha impedido

derechos fundamentales como el derecho de huelga estableciendo servicios mínimos del cien por ciento y haciendo caso omiso a las denuncias puestas por las trabajadoras entre mayo y junio

en esta lucha desigual tenemos a un gobierno que utiliza todas sus armas legales administrativas y coercitivas

la razón de sus demandas la dignidad de su lucha y el ejemplo de su trabajo profesional resolutivo y dando respuesta inmediata a una llamada cada seis minutos que es lo que reciben estas trabajadoras y ante esto

hoy nuestro grupo se vuelve a posicionar del lado de las trabajadoras del lado de su ejemplo del lado de su dignidad y del lado de su coraje y por eso hemos presentado una moción que en el primer punto

en valor el trabajo que realizan para esta sociedad y tenemos que agradecer expresamente al grupo popular y al grupo de eh bildu que hayan entendido que esto no es una moción

y que podemos unirnos todos y todas en favor de un servicio básico y esencial para este país y en favor de las trabajadoras que lo están haciendo día a día bien

en nuestra moción pedimos también en el segundo punto que se respete a este parlamento y a sus decisiones tanto las que nos gustan como las que no nos gustan como hace nuestro grupo

en el contrato anterior y que se implique en un acuerdo entre la empresa y la plantilla para que consigan un convenio propio y para que consigan una remuneración acorde a sus tareas

porque el gobierno a día de hoy es el accionista mayoritario de la empresa adjudicataria del servicio es decir el gobierno se ha adjudicado a sí mismo el servicio de atención telefónica

por eso queremos saber si el incremento de seiscientos mil euros en la partida presupuestaria para este servicio

a los salarios de las trabajadoras o va a ir a incrementar los dividendos de los empresarios y empresarias que comparten la propiedad de lanalde con el gobierno y esta es la cuestión

que la sociedad vasca que es una sociedad tenaz y trabajadora reconoce

que desarrolla las tareas de la sanidad de la policía de la educación y cómo no de la atención de las emergencias y no podríamos entender

que entiende y reconoce este trabajo no podríamos entender que este gobierno no esté a la altura de la generosidad del esfuerzo de la dedicación y la profesionalidad que muestran

humano sostenible aquí tiene una buena oportunidad de poner en práctica ese desarrollo humanos sostenible de hacerlo realidad y de atender

ez zuen errekorridorik eduki baina consejo vasco de la competenciak egin zuen

interpelé a la señora consejera y en la moción que fue consecuencia de aquella interpelación yo señalaba que no era una cerrazón ni un empecinamiento ni de este grupo ni de elkarrekin podemos con relación al

viene de parte del gobierno vasco en la respuesta que se le dio al señor becerra se reconoce por parte de la responsable del departamento de seguridad también se hizo en plenos anteriores que el servicio de emergencias

porque todos hemos dicho eso aquí seguro que los grupos que me van a seguir en el uso de la palabra también

y como decía desde el propio gobierno vasco se dice y es verdad es un servicio esencial porque es un servicio de atención en momentos duros es un servicio de referencia y de calidad pero es un servicio de referencia y de calidad y no se nos puede olvidar

hacer y la profesionalidad de una plantilla rápida y eficaz en momentos difíciles

con una gran implicación y decía que es una plantilla con una gran implicación porque ha realizado una labor que le hubiese correspondido hacer al departamento pero que el departamento no ha hecho y me explicaré lo he dicho en muchas ocasiones y yo no voy a entrar aquí a debatir aunque

el sistema de gestión directa o de gestión indirecta pero

eso hoy aquí pero nuestro grupo es de los que piensa que un servicio público se puede prestar de forma directa por la propia administración o puede sacarse a concurso y ser una empresa la empresa adjudicataria

ni un ápice del carácter de servicio público pero esta moneda tiene otra cara y esa cara es que como tal servicio público es

que funcione bien y la administración tiene que velar por que el servicio funcione por que el servicio funcione bien y que los pliegos con arreglo a los cuales se sacó a servicio se cumplen tiene que velar por que las prescripciones contenidas en la oferta presentada

que en su momento se adjudica el concurso se cumplen y el departamento de seguridad del gobierno vasco no ha cumplido con lo que era su responsabilidad en este servicio

de llevarlo a cabo bien han realizado otro que debiera de haber sido realizado

y se ha demostrado que no se ha cumplido y eso nada tiene que ver con la relación laboral entre empresas y trabajadoras en las que el gobierno vasco dice que no

con el empleo del dinero público el dinero que se paga a una empresa para realizar aquello a lo que se ha comprometido cuando resultó adjudicataria y que no ha realizado y no lo han hecho no han cumplido las prescripciones que estaban contenidas en el convenio no hay reten de guardia no gestionan los perfiles en las redes sociales

y desde el gobierno vasco se ha comprobado esto

estas prescripciones pues no no se ha comprobado porque esto se supone que redundaba en beneficio del servicio no

todas estas cuestiones las hubiera sabido mucho antes el gobierno vasco si se hubiera reunido con las trabajadoras que no lo hizo aún así ellas como digo cumpliendo

han realizado múltiples denuncias han realizado informes del número de personas que en cada turno están demostrando que se incumple el pliego de condiciones

un plus por realizar una función que debiera de haber sido realizada

he señalado en otras ocasiones que el momento de redacción del pliego es cuando era conveniente y necesario recabar los datos para resolver las disfunciones que el mismo presentaba

por eso señalé la conveniencia de la reunión con las trabajadoras pero no se celebró aunque como he dicho estas disfunciones sí que las sabe

y el gobierno vasco ha hecho caso omiso también ha hecho caso omiso de las peticiones de este parlamento de que en el pliego se incluyeran cláusulas sociales cuando yo interpelé a la consejera ya señaló que el servicio debiera de

a quien mejor garantizase la prestación y yo estoy de acuerdo con ello claro que sí lo que discrepo es si va a suceder esto

en la siguiente adjudicación porque el departamento de seguridad como he dicho en otras ocasiones no se ha reunido con las trabajadoras en la contestación que le dio al señor becerra decía que algunas de las cuestiones que planteábamos allí chocaban con la legalidad

para escucharlas para oír de su mano como funciona el servicio qué disfunciones hay cómo se puede mejorar la prestación de ese servicio eso de verdad choca con la legalidad y no se ha hecho pero es que no se ha hecho por parte del gobierno vasco pero tampoco por parte de la empresa

la empresa es verdad que no quiere ni oír hablar de mejoras laborales ni de un convenio específico distinto del telemarketing

quiero señalar lo que en otras ocasiones he dicho aquí más allá de que el gobierno vasco sea el accionista mayoritario de esa empresa más allá de razones de justicia porque no es lo mismo ofrecer un cambio de compañía telefónica que atender a una llamada en situación de angustia como tienen que hacer estas trabajadoras

de un servicio sus condiciones laborales influyen y mucho en la calidad de la prestación de ese servicio por ello sin tener que interferir en esa relación y trabajadores la administración a nuestro juicio en ejercicio de la responsabilidad que le corresponde porque se trata de un servicio público y de un servicio público que debe de funcionar bien

laborales de las personas que prestan ese servicio fuesen las adecuadas porque existen otros servicios de atención telefónica en el propio gobierno vasco

diferentes con relación a la iniciativa nosotros no habíamos presentado ninguna enmienda porque compartíamos los puntos que aquí se establecen evidentemente compartimos ese primer punto que es

un servicio cuyo desempeño implica una valoración especializada y urgente en las llamadas recibidas bajo unas condiciones de alta responsabilidad y estrés

probablemente todos podamos compartir este punto pero poner en valor debe de suponer que esa puesta en valor tenga unas consecuencias porque una declaración que queda muy bien como suelo yo decir alguna vez tipo y la paz en el mundo pues puede está muy bien y que todos estemos de acuerdo con ese punto pero si luego eso no tiene consecuencias ni tiene

en las condiciones laborales de unas personas que como digo su trabajo es muy diferente de ofertar un cambio de compañía telefónica pues esa apuesta en valor creo que se queda muy corta instamos también a poner en práctica los acuerdos adoptados

en relación con la plantilla que atiende el servicio de atención de emergencias yo creo que es cuestión de voluntad política

no tienen no chocan con la legalidad ni nada tienen que ver con la legalidad como decía yo antes reunirse con las trabajadoras hacer de verdad

trabaja para las personas y tiene en cuenta a las personas pues precisamente reunirse con esas trabajadoras sería poner en práctica ese lema y no dejarlo en tal lema como se está haciendo en este momento instamos a mediar

significa suplantar la acción que debe de haber entre empresas y trabajadores no pero sí implicarse en que realmente como digo

en el buen funcionamiento del servicio y el cuarto punto que creo que va de suyo y no debiéramos ni de ponerlo aquí porque vamos

el esperpento el que tengamos que recordarle al gobierno vasco que tiene que vigilar que se cumple la ley

un concurso a una empresa los pliegos de condiciones

eso es ley porque el contrato es ley entre las partes por lo tanto yo creo que en cumplimiento de su responsabilidad y de su obligación

poner en valor este servicio lo que queremos es realmente solucionar independientemente de que puedan surgir también

de unas trabajadoras que consideramos que llevan a cabo un trabajo profesional que llevan a cabo un trabajo en momentos

y desde nuestro grupo queremos poner el granito de arena para que siga funcionando bien y que tengan
unas condiciones acorde al trabajo que desempeñan muchas gracias eskerrik asko llanos anderea

yo ciertamente no sé el resto de los compañeros que han tenido que intervenir antes que yo

a la hora de plantear la intervención dado que ya nos hemos manifestado a este respecto en dos ocasiones esta va a ser la tercera

desde el mes de enero o desde el mes de abril pues no ha cambiado o

manteniendo el mismo discurso que dijimos en enero y que dijimos

oportunidad de que la administración pública introduzca cláusulas sociales en la contratación administrativa que realiza una posibilidad que les voy a tener que recordar que existe gracias a que en la pasada legislatura algunos nos empeñamos en garantizar una ley que ya existe

decir con cláusulas sociales viables aunque otros se empeñaban en que desde este parlamento dictáramos cómo tienen que hacer las cosas otras personas y se empeñaban en que esa ley

niño como la libertad de los agentes en la negociación colectiva de lo que también hemos tenido que hablar hoy en el primer punto de este pleno elkarrekin podemos no estaba entonces pero como en el primer punto que hemos debatido se ha explayado con respecto a lo que se cree que se puede hacer desde una tribuna en negociación

de más recordar cosas simples como esta de que a los parlamentos no nos corresponde la negociación colectiva de las condiciones laborales que eso

cumpliendo ese mandato parlamentario esas cláusulas sociales les guste a ustedes o no y pueden leerse el pliego de condiciones han sido incorporadas por el gobierno vasco en el pliego

seis punto treinta y tres que recoge seis clausulas especiales de ejecución del contrato

el respeto a las condiciones laborales reconocidas a los trabajadores convenio colectivo o las referidas a la promoción de la igualdad de la mujer y el hombre más allá de los criterios de adjudicación que también han sido incluidos el plan de transacción para la subrogación de los trabajadores que actualmente

recoge el convenio colectivo que les es de aplicación asimismo

que ha de realizar la empresa que resulte adjudicataria así como los pertinentes controles a los que ha de someter la empresa durante toda la ejecución del contrato para que haga un exacto cumplimiento del mismo todo esto no les tiene que sonar novedoso porque se lo recordaba y se lo mencionaba en las intervenciones que realicé tanto en enero

preo recordarán todos ustedes que en aquellas dos intervenciones marqué les guste o no les guste y es que hay un marco legal vigente les decía y les leo textual ahora bien

el marco legal vigente y sin que la misma suponga una injerencia en la negociación colectiva que deben pactar libremente la patronal y los representantes de las

para nosotros una cuestión nuclear y que venimos repitiendo en esta cámara en este y otros asuntos que como le recuerdo hemos tenido oportunidad de debatir hoy también

las contrataciones tanto de obras como de servicios que realice el gobierno vasco deben tener como base fundamental el respeto a las condiciones laborales pactadas

y a este respecto es imprescindible que se incorpore en los pliegos de condiciones y así se ha hecho

en la respuesta a la interpelación que dio se ha incorporado como anexo a los pliegos de condiciones el nuevo convenio colectivo firmado apenas hace seis meses por las patronales del sector y por los sindicatos mayoritarios y comisiones obreras es un dato importante y que parecen ustedes

a este parlamento ha habido un acuerdo ha habido un acuerdo

les guste o no les guste este sector de actividad para establecer las condiciones laborales en que han de prestarse estos servicios establecen los convenios colectivos condiciones dignas o condiciones indignas me están diciendo los señores parlamentarios que respetar un convenio colectivo es incluir condiciones indignas

ahora la administración no puede intervenir en ámbitos que no son de su competencia

de intentar que la negociación colectiva sea suplantada por las tribunas parlamentarias

de esa negociación colectiva donde los representantes de los trabajadores y las trabajadoras legítimamente elegidos han exigido han defendido y han logrado pactar un acuerdo con las patronales

un pacto que recoge en su artículo dieciocho la subrogación de los trabajadores en caso de sustitución de las adjudicatarias un artículo que establece las condiciones límites y procedimientos para el ejercicio de este derecho a lo largo de dos extensas un pacto en el que también se regula la formación profesional de los trabajadores de este sector y que también han acordado subidas salariales para el año dos mil diecisiete

estos dos últimos años con referencias al ipc más medio punto uno de los datos que también utilizábamos esta mañana para saber si con eso se va o no

un pacto alcanzado dentro del marco de la negociación colectiva que también recoge el devengo de pluses por idiomas por cooficialidad de lengua por festivo por nocturnidad por transporte todo eso que se reivindica está recogido y que establece un salario mínimo para la categoría no de telefonistas como usted las ha llamado si no de gestores telefónicos porque son algo más que telefonistas

pluses según calendario es decir festivos y nocturnos que dependerá

de las condiciones laborales de las y los trabajadores y que hay un marco propio de relaciones laborales en el ámbito vasco que puede ser utilizado si se quieren mejorar

y yo creo que se equivoca el grupo proponente al intentar nuevamente pretender una injerencia en el establecimiento desde este parlamento de las condiciones laborales por las que ha de regirse

suplantar a los agentes sociales no pueden ni deben desplazar el marco de la negociación colectiva

por cinco veces ahora bien hay puntos de su propuesta con los que sí estamos de acuerdo y que si permite la votación usted por puntos nos gustaría poder respaldar nos referimos a los puntos uno y cuatro para instar al gobierno vasco a que ponga en valor el trabajo que realizan las personas que atienden el teléfono de emergencias ciento doce y por otro lado y lo que nos parece importante para instar al departamento de seguridad a que verifique

escrupulosamente con las condiciones que le han impuesto en los pliegos de condiciones entre ellas el respeto a los derechos laborales que les asisten a estas trabajadoras según su convenio colectivo
muchísimas gracias eskerrik asko castelo

ikusita señor becerra con todo el respeto que sabe que le profeso le tengo que decir que su iniciativa es extemporánea y está desenfocada y se lo digo precisamente porque muchas de las cuestiones planteadas en su iniciativa responden positiva y objetivamente a la acción del gobierno en esta materia a lo que el gobierno se comprometió a hacer

por otro lado señor becerra usted sabe que la tarea principal de esta cámara es legislar

y luego están las funciones de control e impulso a la acción del gobierno sobre la cuestión de la separación de poderes podríamos hablar largo y tendido pero respetando

de impulso en todo momento he de señalar que no es de recibo que esta cámara interfiera tanto en la contratación de un servicio por muy importante y sensible que sea más cuando está en curso ese procedimiento la reiteración en el debate sobre la gestión de una contratación de la administración

en las condiciones de transparencia y sometimiento estricto al marco legal regulador de esta actividad del sector público lo puedo decir más alto

que no lo puedo decir más claro más cuando se trata de un asunto amplísimamente debatido en este parlamento en esta cámara como lo ha recordado la señora castelo con tres iniciativas parlamentarias este año dos interpelaciones y alguna que otra pregunta a la consejera de seguridad dicho esto y en todo caso le pediré que la votación como lo ha hecho la señora castelo se realice punto a punto

votaríamos afirmativamente a los puntos uno y cuatro porque de alguna manera inciden en lo que ya se está llevando a cabo por este gobierno en cuanto al primer punto se refiere a poner en valor el trabajo que realizan quienes atienden el teléfono ciento doce para lo cual se exige una cualificación específica

pues bien la consejera de seguridad ya manifestó en el parlamento vasco

no está en cuestión la capacitación profesional de estas trabajadoras y estos trabajadores al contrario la valoración del departamento es muy positiva

ese servicio se está prestando de una manera muy profesional siempre no lo dude al servicio de los ciudadanos y ello entre otras razones porque la formación que se exige en los pliegos de contratación a las personas que atienden este servicio es exigente

inicial imprescindible según su categoría profesional y una formación continua que redunda en una mejora permanente de su capacitación

protagonismo total al respecto por parte de la academia vasca de policía y emergencias y además se exigen unas auditorías internas y externas que

y se aplica y la remuneración de los trabajadores y las trabajadoras es la fijada por sus condiciones laborales

como mínimo señor becerra las retribuciones fijadas por el convenio colectivo de este sector que ha sido modificado y mejorado este mismo año

publicado en el boe del doce de julio pero cuyos efectos económicos

ahora bien hemos de subrayar la idea de que el departamento no paga a los trabajadores y por tanto

lo que hace es abonar a la empresa contratista las horas de servicio prestadas en función de su número categoría profesional y rango horario es decir sean días laborables o festivos

o nocturno y ya sean teleoperadores gestores o supervisores por tanto otro de los puntos citados en la justificación de esta moción ya incluida

bajas y sustituciones no se puede admitir porque no son trabajadores de esta administración y por tanto no procede crear una bolsa de trabajo una cosa es que este servicio de sos deiakminus ehun eta hamabi

y de responsabilidad pública que lo es y otra cosa que los trabajadores que están contratados por la empresa contratista para la prestación de ese servicio sean empleados públicos

no son empleados públicos la provisión de trabajadores en los supuestos de baja laboral corresponde a la propia empresa contratista y no señor becerra

a la administración que no mantiene ningún tipo de relación laboral con esos trabajadores ni ejerce poder alguno de dirección o de jefatura laboral sobre ellos en cuanto al cuarto punto se refiere a que el departamento de seguridad verifique de forma fehaciente el cumplimiento de las condiciones recogidas en los pliegos

cabe decir aquí que no es necesario que se le inste al departamento a realizar esa verificación

el cumplimiento estricto durante la ejecución del contrato de lo establecido en los pliegos y de los compromisos adquiridos por la empresa adjudicataria y de ello se encargan habitualmente tanto los servicios técnicos de la administración como sus responsables así se hace habitualmente y así se ha hecho hasta ahora en el servicio de atención de

se continuará haciendo con cualquier empresa que sea la contratista de ese servicio

con los puntos segundo y tercero en el punto segundo se refiere a que el gobierno vasco ponga en práctica los acuerdos adoptados sobre las condiciones laborales de la plantilla se trata de la enmienda transaccional

los grupos parlamentarios de eh bildu elkarrekin podemos y el partido popular dijimos entonces que la proposición no de ley aprobada el pasado veintiséis de enero

y un brindis al sol en algunos de sus apartados no era aplicable a este servicio porque no lo permitía la normativa jurídica de contratación pública

las normas de contratación y la jurisprudencia de los tribunales han establecido que la subrogación de los trabajadores no se puede imponer por la administración pública a través de los pliegos de contratación si hay o no hay obligación de subrogar eso lo deben establecer las normas laborales

o los respectivos convenios colectivos el departamento de seguridad sí ha hecho todo lo posible para que los trabajadores mantengan sus condiciones laborales

eso sí dentro del campo de juego que nos dejan las normas de contratación hay unas cuantas medidas fijadas en los pliegos a favor de los trabajadores no las voy a detallar ya lo ha hecho profusamente la señora castelo pero todas estas medidas se hacen con el fin de evitar

los precios que ofertan en claro perjuicio para las retribuciones de sus trabajadores y nuestros argumentos señor becerra son argumentos legales

al tercer punto se refiere a que el gobierno vasco se implique y medie entre la empresa y la plantilla al objeto de que pueda acordar un convenio

este objetivo no puede ser atendido por el gobierno por varias razones en primer lugar

en un ámbito que corresponde exclusivamente a las empresas y a los trabajadores la administración pública

en la negociación de las condiciones de trabajo que las partes pueden y deben negociar entre ellas

si el gobierno intentara mediar podría ser acusado por una de las partes por cualquiera de las partes sea la patronal o sean los sindicatos de favorecer o de plegarse

participar en la negociación de las condiciones laborales de trabajadores que no forman parte de su plantilla además el estatuto de los trabajadores y en general la normativa laboral ya contempla formulas

y a dichos cauces y a dichas fórmulas se debería acudir esa es la postura del grupo nacionalista en relación con la moción presentado por el grupo elkarrekin podemos relativa al servicio

por las razones expuestas los puntos uno y cuatro de la moción son asumibles los puntos dos y tres no los son eskerrik asko

este parlamento no interfiere en la contratación de los servicios públicos

mis compañeras parlamentarias lo han dejado bien claro la señora ugarte ha puesto en evidencia que una gobierno puede introducir cláusulas sociales y que es perfectamente legal introducirlas otra cosa es que se quiera o no se quiera mi compañera la señora llanos

que se han ido aprobando en estos meses ha habido algunas que han sido perfectamente cumplibles y tampoco se han cumplido

es responsabilidad de este parlamento fiscalizarlo y dejarlo en evidencia

han sido falsos y han hablado de la ilegalidad de determinadas condiciones fíjense la única ilegalidad que se está cometiendo ahora mismo la está cometiendo el departamento de trabajo poniendo unos servicios mínimos del cien por ciento

el tribunal supremo ha dictaminado que unos servicios mínimos del cien por ciento en el ciento doce vulneran el derecho de huelga el tribunal supremo

pregunte en su departamento por qué están incumpliendo ustedes la ley expresamente y ya de paso

no han sido respondidas pregunte en qué cajón están metidas

no antes es una cuestión de voluntad política y lo ha dicho la señora llanos que se mejoren los pliegos que se implique el gobierno

lo único que pretende el gobierno con esta cuestión es no crear un precedente un precedente que deje en evidencia

la externalización de los servicios a día de hoy ustedes han dicho que van a aprobar dos de los cuatro puntos de la moción qué van a aprobar ustedes la primera que van a aprobar es

instar al gobierno a que la remuneración de las trabajadoras sea acorde a las tareas que desempeñan usted señor latxaga ha dicho que el gobierno tiene una valoración muy positiva del trabajo de estas personas tiene también una valoración muy positiva de su remuneración

le parece acorde al trabajo que realizan porque ustedes están votando que sea

euros brutos es acorde a la tarea esencial que están desempeñando estas trabajadoras

están ustedes reconociendo que en el último contrato no se ha controlado

pueden votar a favor o no pero eso es lo que están votando están diciendo ustedes que se ha incluido en el último pliego el convenio que les es de aplicación el convenio que les es de aplicación el de contact center es el convenio de telemarketing el convenio que les es de aplicación a estas trabajadoras es este

principal problema que vino aquí es precisamente derivado de eso de que están haciendo un servicio que es esencial y si es un servicio esencial se puede atender con un convenio de telemarketing

un convenio específico para el ciento doce y hay aquí en euskadi convenios como el de ambulancias

o se asimila más al trabajo que están haciendo no han incluido ese convenio han incluido ustedes de nuevo el convenio de telemarketing que es el que no es aplicable

ha dicho la señora llanos que lo importante es que el servicio funcione bien claro pero

sino gracias al empeño y a la profesionalidad de las trabajadoras y eso tiene que quedar claro se está haciendo un buen servicio pese al gobierno pese al gobierno

si algo he dejado yo aquí claro es que la patronal en este caso es el gobierno porque lanalden

tiene como propietario al gobierno en un treinta y tres por ciento del accionariado a través del fondo hazilur

económico y competitividad perdón e infraestructuras es el gobierno la patronal por eso puede mediar por eso puede mediar no por otra cosa

y va a ser difícil y termino ya señora presidenta que podamos traer una cuarta vez esta cuestión y posiblemente tampoco es deseable pero lo que sí me gustaría es aprovechar mis últimas palabras para animar a las trabajadoras a seguir en su lucha porque luchar por la dignidad con el coraje que lo están haciendo

hace digno a este parlamento y también hace digna a esta sociedad porque una sociedad mejor y más justa con un desarrollo humano sostenible solo se consigue cuando las trabajadoras
pelean por sus derechos y lo hacen con la dignidad con la que lo están haciendo ustedes muchas gracias eskerrik asko

gracias de nuevo señora presidenta decía la señora castelo que

que no sabría qué decir yo le recomiendo que hable usted con el señor itxaso que había cuestiones que

trayendo muchas veces y nosotros considerábamos

y mire como dice ese dicho yo amenazo con volver porque es un tema lo suficientemente importante que afecta primero a un colectivo de personas

y segundo que si no se cumple lo que se realiza más allá de aprobar todos el primer punto y reconocer la valía

a traer el tema porque no lo consideramos trasnochado en absoluto señor latxaga usted nos ha llamado extraños compañeros ahora de cama

ahora es de cama no sé como sigamos así de qué vamos a ser

lo que ocurre es que señor latxaga parece que los binomios no son extraños si ustedes participan en esos binomios en cuanto el partido nacionalista vasco

y mire yo coincido con el señor becerra en este asunto pero porque me parece de justicia los planteamientos que me han venido a realizar

no solamente las he defendido las llevo defendiendo las distintas instituciones en las que he realizado y por si tiene usted la tentación como luego no le puedo contestar le voy a decirle que en otras comunidades autónomas mire yo no sé lo que pasa en otras comunidades autónomas pero yo estoy aquí en euskadi

y cuando unas trabajadoras no se les dan las condiciones que a nuestro juicio debieran de tener

de un servicio público que yo comparto con ustedes que un servicio público esté gestionado a través de una empresa no le quita el carácter de público

para que funcione bien y que para que el pliego de condiciones con arreglo al cual

porque las trabajadoras se lo han demostrado que no se ha cumplido al gobierno no lo han podido decir de viva voz verdad porque la agenda estaba

recibir nadie pero se han encargado a través de zuzenean hacerles llegar y por cierto lo del cien por ciento existen en otras comunidades autónomas en las que cuando se han decretado los servicios mínimos pues han sido el ochenta y cinco por ciento

el ochenta y cinco por ciento y nosotros claro que pedimos que se respete la ley pero es que se lo he dicho antes yo creo que hay fórmulas a través del respeto de la ley si hay voluntad política

que yo le pregunto usted cónsteseme sinceramente sin usted cree de verdad que venderle a una personas un cambio de operador telefónico por ejemplo que

o venderle un producto bancario su desempeño y su labor es la misma a quien usted está llamando me da igual porque

caso y le está contando qué tiene que hacer y a quien puede mandar de verdad cree que eso es lo mismo

esa diferencia porque somos muy europeos pero en otros países de europa que se aplica es verdad el convenio telemarketing sin embargo las remuneraciones un operador un gestor que está vendiendo un producto telefónico y un gestor de emergencias son diferencias salariales del treinta por ciento y claro que el gobierno vasco puede

y más en este caso como le ha dicho el señor becerra que dispone de una parte importante de esa empresa que es que una parte importante de la empresa adjudicataria del servicio está participada por el propio gobierno vasco no me diga usted que no puede implicarse en la mejora del servicio

que las condiciones laborales sean buenas que se cumpla el pliego de condiciones

con las personas que están desempeñando ese trabajo más allá de esa justicia y aquí la señor castelo decía que no se puede en ningún caso un gobierno en la negociación colectiva que yo no he dicho que se ponga a negociar con los convenios colectivos con las trabajadoras no lo he dicho en absoluto yo vengo a reclamar lo mismo que ustedes hacen en otras ocasiones

pide que se implique para lograr un acuerdo justo entre patronal y sindicatos de estibadores

y pide al gobierno que intervenga en el conflicto laboral que enfrenta a la empresa adjudicataria del servicio a bordo de los trenes de ave y la empresa ferrovial lo mismo lo mismo es lo que estamos pidiendo aquí pero le digo una cosa señora castelo si dentro de cuatro años ustedes pasan a la oposición

para ponerse delante y detrás de la pancarta de verdad que es admirable muchas gracias eskerrik asko

decía el señor becerra que la compañera de bildu y la compañera del partido popular bueno pues mire usted la compañera de bildu que le acompaña aquí

en este reconocimiento de condiciones laborales en una subcontratación cuando tuvieron la posibilidad de decidir

cuando ellos gobernaban y tenían la capacidad de decidir para no privatizar un servicio en concreto el servicio telefónico de atención del servicio de transportes en la diputación de gipuzkoa lo privatizaron y cuando tuvieron que defender las condiciones laborales de los trabajadores de ese servicio les aplicaron el convenio

bueno esa es una de las compañeras de viaje que usted se trae en este tema la otra compañera de viaje que usted se trae en este tema es la señora del partido popular

cuando se sale y se dicen las cosas porque si en este momento hay un problema en la negociación colectiva en españa no solo en el país vasco tiene que ver con una decisión adoptada en mayoría absoluta por el partido popular en la reforma del año dos mil doce que desequilibró totalmente la situación

dándole todos los instrumentos a la patronal con lo cual está muy bien hacer eso

y luego venir aquí a esta tribuna y sumarse con usted a reivindicar condiciones laborales

por lo menos y lo decía yo esta mañana tienen la cobertura de un convenio colectivo de aplicación y no les pueden aplicar el salario mínimo interprofesional como le está pasando a otros colectivos

establece que se aplica a los servicios de atención de llamadas telefónicas en emergencias y que por cierto

los gestores de emergencia son grupo nueve con una retribución diferente a lo que son gestores de seguros que están en otra categoría profesional y por tanto también hay una retribución

no están incluidos ahí los pluses ni de nocturnidad que a usted le puede servir la reivindicación que ella dice pero el plus de nocturnidad está establecido en

trabajado es lo que dice el convenio colectivo y si la empresa respeta ese importe podrán querer reivindicar más cantidad y lo tendrán que hacer en legítima defensa de sus derechos pero tendrán que conseguir un acuerdo para que se les pueda aplicar una cantidad superior

o va establecer el gobierno vasco en sus pliegos de condiciones cuánto es el plus que tienen que cobrar

vamos a ser nosotros si yo lo único que le digo es que no podemos hacer eso

y no dar alas donde se sabe que no tienen yo lo único que les digo es que aquí

vigilar que esto se cumple y que estos son los derecho que ellas

tendrán que intentar tener un convenio colectivo de empresa y pelearlo donde pueden hacerlo en la negociación colectiva entre la empresa y las trabajadoras

ellas organizar para conseguir mejores reivindicaciones de las que este convenio firmado hace seis meses recoge para tres años a esta tribuna podrá venir cuantas veces ustedes quieran cuantas veces pero yo no podre cambiar lo que les estoy diciendo en este momento y me parece de un cierto cinismo político que se diga aquí

en la que usted preguntó para que se le respondiera por escrito con respecto a los controles que se realizaban a la empresa y se le dio una contestación que la tendrá usted igual que la tengo yo que concluye de la siguiente manera ni lo ha mencionado y le daba los datos de los dieciocho cursos ejecutados le estaba diciendo

cómo se ha controlado los controles de presencia en cobertura de servicio ordinarios y de refuerzos y le decían también cómo se hacía también el tema de los oyentes del personal de del personal directivo y concluía todo ese informe

en una cosa que dice los servicios técnicos

no han detectado incumplimientos de las condiciones de adjudicación del mencionado contrato usted lo sabe

de la web el pliego de condiciones y usted ve que ahí se ha recogido que tiene que ser respetado el convenio colectivo del sector y ahí también sabe usted que se recoge la subrogación una de las cuestiones que pedían las trabajadoras y se recogen todas las condiciones laborales que se han

está muy bien que se nos venga a aplaudir pero está muchísimo mejor muchísimo mejor

a problemas complejos en este caso concreto yo entiendo que su grupo o usted mismo

a algún colectivo o grupo y ofrecer ese tipo de soluciones soluciones sencillas pero la realidad es tozuda

la realidad es que si hay algo tasado esos son

y usted lo sabe porque como dijo el otro día aquí en esta cámara en la interpelación que le hizo a la consejera lo ha sufrido en sus propias carnes

adscritos a diversos órganos y a diversos servicios lo recomendable para todos entonces

no inmiscuirse en exceso en cuestiones relacionadas con el proceso de adjudicación lo que no me parece bien y le tengo que afear la conducta es lo que usted hizo el pasado uno de diciembre en la mencionada interpelación

dijo que el contrato estaba ya adjudicado y en segundo lugar relacionó a la empresa adjudicataria con sabin etxea la iglesia católica

y el propio gobierno vasco para la conspiración perfecta

y el bbva por favor no utilice esta cámara porquería basura sobre nuestros escaños no lo utilice para eso hágalo para cosas más edificantes y no lo haga de forma gratuita sin ningún de prueba lo que usted decía era muy grave muy grave y no

así por así en esta tribuna si quiere acusar a alguien de prevaricación si quiere acusar a alguien de prevaricación y no se atreve

es su problema si tiene alguna prueba no basada en cuchicheos o en dimes y diretes tiene un juzgado de guardia muy cerquita de aquí y acuda a él para interponer

leo esta mañana que la real academia de la lengua incluye o admite en su diccionario una panoplia de términos que se han puesto de moda en el lenguaje cotidiano en los últimos meses y años

tres términos tres palabras son buenismo postureo y posverdad sinceramente creo que los tres

términos definen en cierta medida con diferentes grados de intensidad eso sí la postura mantenida en torno a este asunto

sí muchas gracias presidenta buenos días señoras y señores parlamentarios

oyendo a la señora ubera pues parece que no se hace nada o parece que todo está por hacer y no es verdad no es verdad porque yo creo que

es una normativa que facilita el que haya deporte escolar y de que se ejecuten programas de deporte escolar bien seguramente que manifiestamente mejorables seguramente pero que están ahí no sobre la mesa

la que resuelva algunos de los problemas que pueden ser nosotros sí que compartimos la preocupación por el desarrollo del deporte escolar como por supuesto pero yo

escolar que tenemos señora ubera no discrepamos de él independientemente de lo que

de reflexión o un proceso previo a una reforma legal una normativa y seguramente pues ese congreso esas jornadas a las que usted citaba hayan servido no pues para enfocar algún cauce de reforma normativa si cabe perfeccionar el modelo pero nosotros sí que con el modelo y con implicación de los órganos forales en el deporte escolar estamos plenamente de acuerdo nosotros

no queremos lo que usted dice que es el fondo el fondo de su intervención

el deporte escolar creo yo como lo que usted dice que es rescatar competencias por parte del gobierno vasco de las diputaciones forales en ese neocentralismo en el que usted se mueve en relación con esta comunidad pues nosotros con eso no estamos de acuerdo nosotros estamos de acuerdo con el modelo con el modelo de implicación foral

somos defensores del modelo de intervención tal y como está planteado en la materia de las diputaciones forales que contempla la normativa citada la ley del noventa y ocho

no queremos apartar a las mismas de la programación que es la competencia que tiene atribuida

la normativa actual desde nuestro punto de vista garantiza un buen cauce de organización desde luego que es posible que sean mejorables es decir sí que hay diferencias

el modelo y la organización y los consejos y las personas y las administraciones que trabajan en esa coordinación pueden ser capaces de mejorar de buscar las fórmulas para su aplicación

entendemos que el sistema es correcto además como decía antes es que oyéndole parece que no se hacen no no es que se ha trabajado se trabaja y se trabaja duro independientemente de que igual

que vea y haya algunas limitaciones en lo que es la colaboración entre el gobierno las diputaciones los ayuntamientos que sean manifiestamente mejorables seguro que sí

de ir progresando pero esta prevista señora ubera una reforma de la ley del deporte del país vasco y ese será el cauce y las enmiendas y desde luego que usted pueda presentar y que nosotros podamos debatir seguramente

debate constructivo pero nosotros no vamos a trabaja por cambiar el modelo nosotros no vamos a trabajar

y nosotros queremos esa implicación de lo que ahora existe y yo creo que

pueden quedar en un voluntarismo a la hora de decir una cosa en primer lugar y hacer otra usted lo que quería era que el gobierno vasco y el modelo

fuese asumiendo y vaya asumiendo progresivamente lo que tienen son competencias de otras entidades como las diputaciones forales a modulado lógicamente veía que no iba a sacar

pero en cualquier caso no estamos de acuerdo nosotros preferimos

que hemos firmado con el grupo socialista y con el grupo nacionalistas vascos porque se centra en

independientemente de entender que pueda ser mejorable desde nuestro punto de vista nosotros es una buena regulación se podrá mejorar

y ahí será donde se pueda encontrar un cauce de perfeccionamiento de perfeccionamiento del modelo no de cambio de modelo de perfeccionamiento del modelo de organización del deporte escolar y de las competencias que la ley

y que habla de lo que habla es decir cuando habla de los programas aprobados por los órganos forales cuando dice que los requisitos de las diputaciones forales para autorizar la organización de competiciones la colaboración activa de esas diputaciones con

escolares con los centros deportivos municipales es decir eso es lo que nosotros queremos seguir fortaleciendo y reforzando y por eso hemos presentado una enmienda de transacción donde hablamos de esas cuestiones también recogemos la primera parte de su iniciativa como

de salud no cabe ninguna duda eso lo hemos reconocido desde el primer momento es posible que por ahí sea bueno que en la nueva normativa sobre el deporte escolar

y de algunas de esas características del deporte escolar que hoy no quedan reflejadas en la actual normativa pero eso no reforzar lo que pueda ser de bueno del modelo que tenemos actualmente

esos órganos interinstitucionales donde están los directores de las diputaciones forales

con el resto de instituciones o del resto de entidades y centros educativos llamados a participar y también

que hay que continuar trabajando en la formación reglada y la financiación del deporte escolar eso sí que es cierto hay una cuestión que sí que

de crisis ha habido recortes en materia deportiva eso es patente en

y en el gobierno vasco en la materia deportiva y la dirección de deportes

hay que recomponerlo pero volvemos a decir es una cuestión de trabajo en este momento no es una cuestión de cambio de modelo

en la ley y desde luego nosotros en esa ley mantendremos el modelo pero perfeccionaremos

que usted ha dicho muchas gracias eskerrik asko barrio jauna elkarrekin podemos garcía andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea hoy debatimos una temática el deporte escolar que como tantos otros ámbitos de la esfera social y educativa debe de adaptarse a los nuevos tiempos

desde nuevos parámetros y es que a pesar de que el deporte escolar ocupa un espacio no curricular encierra un elevado potencial formativo y educativo por ello adquieren especial relevancia las relaciones entre las actividades curriculares y las extracurriculares

y de su interrelación depende que el centro cumpla su misión que no es otra que el desarrollo personal y social del alumnado de hecho en la actualidad se puede decir que hay más de escuela fuera de ella que dentro en este sentido el deporte escolar emerge como un valor irrenunciable ante un sistema educativo

especializado y aplicado más allá de que ese conocimiento descanse en personas humanamente sólidas enriquecedoras y enriquecidas por una formación integral

el deporte escolar tal y como exponen diversos investigadores investigadoras del instituto de estudios de ocio de la universidad de deusto en un momento de profunda crisis económica y también de valores el deporte escolar se perfila como uno de los ámbitos especialmente idóneos

con inquietudes diversas y dispuestas a crecer no únicamente en el contexto profesional sino también en otras vertientes de la vida por otro lado

que reitera las potencialidades del deporte en general y del deporte escolar en particular

bien es sabido que el deporte escolar puede desempeñar un papel decisivo en la vida de las personas pero sobre todo su impacto puede ser crucial entre niños niñas y jóvenes por una parte en cuanto a vía de desarrollo físico intelectual emocional y social y por otra la huella emocional

en la definición de sus historias de vida así como en la presencia o ausencia de la práctica deportiva en dichas trayectorias no lo décimos nosotras sino las personas expertas en el estudio de esta temática existen diversas y numerosas opiniones especializadas que abundan en los beneficios de la práctica deportiva escolar como fuente de salud integración cooperación y superación sin embargo también se hace cada vez más patente que si esta práctica escolar

cuya experiencia personal sea socialmente esté marcada por la desigualdad la violencia la exclusión o la rivalidad mal entendida de ahí la enorme importancia de las y los agentes sociales significativos pues dependiendo de la orientación que den a la práctica deportiva escolar

en este contexto se remarca la importancia de trabajar el deporte desde un ámbito educativo en el que además de enseñar técnicas y tácticas deportivas también se dote

y jóvenes de base en torno a los valores es cierto que durante las últimas décadas el deporte escolar ha tenido respaldo institucional que ha supuesto la puesta en marcha de numerosos programas y la oferta de un rico panorama de alternativas acorde

del colectivo escolar sin embargo la constatación de estos avances no es óbice para negar que el deporte escolar

de la difícil coyuntura económica social y política que continuamos viviendo en este sentido en cuanto el fenómeno es un fenómeno complejo con implicaciones diversas el deporte escolar demanda un análisis holístico capaz de abordarlo

sino desde otros parámetros que lo enriquecen y descubren nuevos matices susceptibles de contribuir a la mejora según el estudio aportaciones al modelo del deporte escolar en el territorio histórico de bizkaia elaborado por el instituto de estudios de ocio

es decir en otro contexto se planteaban dos retos retos ligados al territorio de bizkaia pero fácilmente extrapolables al resto de la comunidad posicionar el deporte escolar como referente educativo de calidad y dos optimizar el potencial de las y los agentes implicados en los programas del deporte escolar

diez objetivos elaborar un plan estratégico de deporte escolar

así como los principales retos a abordar durante los próximos años iniciar una coordinación con los y las agentes deportivos implicados un proceso de revisión de la oferta del deporte escolar

persistir en el fomento de la participación en el deporte escolar de la población escolar

para favorecer su contribución al desarrollo personal y social de toda la población escolar establecer mecanismos de evaluación y mejora continua

en los diferentes niveles administrativos para hacer viable la cooperación y el trabajo conjunto

fomentar estrategias y dinámicas necesarias para favorecer la coordinación entre agentes adoptar las medidas necesarias para ejercer el liderazgo y la coordinación desde las diputaciones

adecuar el nivel formativo y propiciar el reconocimiento social del papel de los y las agentes implicados en el deporte escolar

del deporte escolar en la ciudadanía vasca dando a conocer sus aportaciones a la formación integral de la población escolar y el desarrollo social y económico del territorio

a la iniciativa presentada por euskal herria bildu era simple y llanamente instar al gobierno vasco a elaborar en el plazo de seis meses y contando con la participación de la comunidad educativa y agentes directamente implicados en el deporte escolar un estudio con el objetivo de disponer de un diagnóstico actualizado del deporte escolar en euskadi si estamos hablando de la adaptación del deporte escolar a los nuevos tiempos en el ámbito educativo

tener información actualizada para que estas acciones respondan adecuadamente a la realidad en este sentido desde elkarrekin podemos consideramos que el reto de fondo está en repensar conceptualmente el deporte escolar desde nuevos parámetros y repensar el cómo para hacer del deporte escolar

los agentes sociales y el sistema en su conjunto una de las críticas más reiteradas al deporte escolar desde hace décadas es la supuesta distancia que separa en muchos de los casos

del deporte escolar de su praxis esta brecha entre concepción y realidad se perfila como uno de los problemas más acuciantes del deporte escolar y el origen de buena parte de las dificultades

la comprensión y apropiación del concepto de deporte escolar no desemboca en interpretaciones ni significados idénticos entre los diferentes agentes del deporte escolar como hemos dicho anteriormente

se encuentra mal orientada puede generar actitudes comportamientos y experiencias personal y socialmente poco deseables marcadas por la violencia física o verbal la discriminación

la enorme importancia de la formación de los agentes sociales significativos protagonistas del deporte escolar pues dependiendo de la orientación que den a la práctica deportiva pueden derivarse de ella retornos de muy distinto valor y significado dicho desajuste desemboca en la comunidad científica en una conocida polémica que enfrenta a dos modelos de deporte escolar el competitivo versus el participativo

en las actividades deportivas bien hacia el resultado o hacía la participación subyace a esta dialéctica un discurso fuertemente arraigado

y sitúa a los agentes que los representan en un continuo de valor positivo o negativo

y el participativo la positiva pero el problema de fondo del deporte escolar no se agota en la oposición entre el modelo participativo versus competitivo ni tampoco en la decisión acerca de qué agente debería tener más peso en la intervención en el deporte escolar

porque la oposición participación competición no hace justicia a la naturaleza ni a las posibilidades reales de la práctica deportiva escolar participación y competición no son palabras antónimas pues bien enfocada la segunda puede perfectamente formar parte de la primera de hecho volcarnos en la primero opción en la participación no debería suponer necesariamente

aunque puede variar en este caso el sujeto o el objeto con el que se compite con uno mismo con el entorno etcétera igualmente presuponer que la orientación a la participación implica obviar la esencia del deporte asociando a esta expresiones lúdico deportivas

dedicación y búsqueda de mejora de habilidades denota una visión reduccionista del fenómeno deportivo y también del ocio en segundo lugar porque es importante recordar el papel central en el desarrollo del deporte escolar en cuanto que la comunidad educativa constituye

para la participación deportiva en definitiva este gobierno tiene la responsabilidad de adaptar el deporte escolar a los nuevos tiempos en el ámbito educativo por eso apoyamos la iniciativa de euskal herria bildu y contribuimos al debate

de que este repensar esté ligado a la importancia de las aportaciones del deporte escolar a la satisfacción bienestar y calidad debida del colectivo escolar

trascienda su valor educativo para vincularlo al desarrollo humano tal y como apuntan informes internacionales como

como ya ven no nos sacamos este cambio de modelo de la chistera sino que es una necesidad del propio sector eskerrik asko eskerrik asko

que en cierto modo se ha debatido ya en la comisión de cultura euskera y deportes

de noviembre tuvo lugar la comparecencia del consejero de cultura a fin de explicar el nivel de cumplimiento del decreto ciento veinticinco barra dos mil ocho de uno de julio sobre deporte escolar y esta misma semana en comisión se ha debatido una proposición

del deporte escolar el debate de hoy se centra en un aspecto muy concreto ubicar o encajar este decreto el dos mil ocho sobre deporte escolar en el ámbito educativo

del deporte del país vasco en su título quinto que se ocupa de uno de los motores de todo el sistema deportivo

como sabemos está en marcha el proyecto de ley de acceso y ejercicio de profesiones del deporte del país vasco sabemos que se está trabajando y que se ha puesto en marcha esa nueva ley que dará respuesta a muchas de las preguntas como a la formación reglada del deporte escolar pero no solo el proyecto de ley de profesiones deportivas podrá dar respuesta sino que también tenemos que tener en cuenta

porque ambas encajan en ese marco y esto es algo que no es competencia nuestra no es competencia del departamento de educación

del consejero de cultura y política lingüística pero evidentemente afecta a educación porque es una parte fundamental del deporte escolar y del sistema educativo

la adaptación del deporte escolar en el ámbito de la educación aquí es donde entran nuestras competencias y desde donde debemos hacer frente a los objetivos y desarrollarlos teniendo en cuenta

como a de impartirse también el deporte escolar aquí es donde las fuerzas políticas debiéramos de tener

en el pacto educativo como en el proyecto de ley de profesiones deportivas como la nueva ley de deporte del país vasco en todas ellas se deberá abordar el deporte escolar con una concepción totalmente diferente porque el decreto ciento veinticinco barra dos mil ocho establece que el deporte

para el desarrollo armónico de su personalidad y para la consecución de unas condiciones físicas y una formación que posibiliten la práctica continuada del deporte en edades posteriores

se considera deporte escolar aquella actividad deportiva practicada por escolares en horario no lectivo si queremos adaptar el deporte escolar al ámbito educativo

recomendación general del ararteko dos barra dos mil dieciséis de dieciséis de febrero establece y fija cuáles son los valores que deben de garantizarse por parte del deporte escolar

se parte de una concepción del deporte que va desde luego mucho más allá del deporte de competición se centra en una nueva formación en valores de la sociedad vasca

como en el punto de vista de integración y cohesión social como también en la mejora de la salud pública

a la educación integral de niños y niñas garantizando su acceso y participación en condiciones de igualdad y al margen de estereotipos y roles en función de sexo lugar de residencia recursos económicos procedencia social y geográfica idioma o cualquier otro condicionante que pueda menoscabar la igualdad de los menores se debe igualar al mismo nivel el hecho de ejercer la actividad física

y las administraciones deben de ser conscientes de cuáles son sus obligaciones y velar por los principios que rigen el deporte que practican niños y niñas

competencias el deporte escolar en el ámbito de la educación tiene que ir dirigido a la educación en valores a completar el desarrollo educativo del niño o niña que lo practique

ni en rivalidad sino en el desarrollo de las capacidades en el desarrollo del respeto y de la igualdad en la tolerancia y en el compañerismo fomentando la cohesión social porque además el deporte escolar ayuda a niños y niñas a prevenir también

la señora ubera se ha marcado el gobierno vasco un plan para combatir la obesidad está previsto implantar ese plan de prevención

dándole simplemente una marca propagandística es importante que eso se recoja también entre otros aspectos de la educación pero está claro que en el ámbito educativo no debe ser considerado el deporte como una actividad física reglada

tiene que ser un medio para educar y formar a los jóvenes a través del movimiento hemos presentado una enmienda con el grupo socialista y el partido popular que manifiesta que el deporte escolar es elemento de salud integración social

por encima del género orientación sexual lugar de residencia recursos económicos procedencia social y geográfica

que pueda menoscabar la igualdad efectiva de los menores y se insta al gobierno vasco

políticas y medidas para la defensa y el desarrollo de los niños

tan dentro de su desarrollo personal texto muy parecido al primer punto que presentan ustedes el parlamento a la luz del decreto al que hacíamos referencia

insta ya al gobierno vasco para que la comisión vasca del deporte como órgano institucional integrado por los directores de deportes de los órganos forales

y adopte medidas para que entre otras se implique en el liderazgo de la planificación el seguimiento y el desarrollo del deporte escolar a los centros educativos trabajando de forma permanente

a los nuevos tiempos y en consonancia con la recomendación del ararteko a la que hacíamos referencia sobre necesidad de que el deporte practicado en edades previas al deporte escolar se base en valores educativos y no competitivos el parlamento insta al gobierno vasco

educativa y deportiva con los ayuntamientos del país vasco incida especialmente en que estos sigan garantizando que las actividades deportivas organizadas para niños y niñas y en particular en esas edades previas que decía el ararteko

participativos y no competitivos y por último se insta al gobierno vasco a que a la hora de promover un modelo de calidad de juego actividad física y deporte del periodo escolar

todas las etapas buscando espacios de colaboración y consenso con el resto de instituciones para continuar trabajando en la formación reglada y la financiación del deporte escolar prestando especial atención a la colaboración para la mejora de políticas por la igualdad efectiva de mujeres

es la que dice la señora ubera de reclamar la competencia para educación en esta materia porque probablemente esta discusión tiene mucho que ver con este complejísimo

a esta serie de disfunciones pero en cualquier caso no quiero acabar sin volcar una serie de consideraciones sobre lo que pensamos los socialistas vascos a este respecto y a nosotros nos parece que el programa no es solo un programa deportivo

sino que evidentemente es un programa con una clara orientación pedagógica y aquí se les educa en valores o se le debe de educar y se les debe de dotar de destrezas y habilidades específicas

a través del deporte pueden adquirir habilidades psicomotoras sociales y personales y para ello y queremos reclamarlo aquí es necesario una mayor implicación del departamento de educación del gobierno vasco porque nos parece que hay tres aspectos

del departamento de educación es capital el primero la eliminación de la brecha de género que existe en la práctica deportiva el segundo la eliminación de la brecha socioeconómica y el tercero la eliminación de la desigualdad en el acceso o en la práctica

pueden ser discriminados o que tienen problemas de discapacidad que también se puede dar el caso y para que este programa sea inclusivo y justo

se comprometa de verdad con el deporte escolar para dotarle de los mismos sistemas de protección que dispone un aula en la enseñanza reglada yo quiero decir que lamento sinceramente que no haya sido posible que hayamos alcanzado un acuerdo en un tema tan sensible como este pero estoy seguro y desde luego ese va a ser el empeño del partido socialista que en un futuro próximo ese consenso sea posible

tenga el lugar que le corresponde dentro también del departamento de educación eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak gurrutxaga andrea zurea da hitza

en ese sentido sí que está repensando como decía la señora garcía que sí que está repensando todo el modelo hasta ahora cómo ha funcionado y está contando además con los respectivos eragileak para abordar todo este tema y poder

de una manera más eficiente y que todos nos podamos sentir más cómodos

barrio jaunak dauka hitza bertatik sí muchas gracias señora presidenta con su permiso desde el escaño

señora ubera tenemos normativa y tenemos una buena normativa o sea que no hay que cambiarla vale pues de acuerdo

el título quinto de la ley del deporte del noventa y ocho

pues en eso estamos de acuerdo pero entonces por qué su iniciativa es de cambio de modelo eso

de recuperar competencias es decir de desarmar una de las competencias una de las capacidades o de las actuaciones políticas ahora que llevan las diputaciones forales pues eso no queremos

efectivamente si usted habla de mejorar si usted habla de arreglar desequilibrios que puede haber entre los tres territorios históricos pues efectivamente si además era la responsabilidad

pero lo que está bien claro y lo que ha quedado bien claro en este debate independientemente de que votemos distinto es que el modelo normativo

que no se cumpla la ley en ese sentido si el modelo normativo es correcto lo que usted pretendía con su proposición inicial

el hecho de que el deporte escolar pueda ser programado por las diputaciones forales no es ninguna disfunción muchas gracias

legebiltzarkideok estamos en el quinto y último punto del último pleno ordinario del dos mil diecisiete y realmente celebramos que estemos cerrando

este acuerdo un acuerdo que se suma a tantos otros que hemos logrado alcanzar para avanzar en la igualdad y erradicación de las violencias machistas desde elkarrekin podemos asumimos desde el inicio el compromiso y el desafía de impulsar un cambio cuantitativo

estamos convencidas de que vivimos en un tiempo en el que toca dar un salto y este año ha estado repleto de señales que así nos lo indican

tomar buena nota del aumento constante y muy significativo en el número de denuncias también del movimiento contra el acoso sexual del yo te creo

de las movilizaciones multitudinarias tenemos que tomar buena nota

en las políticas de igualdad algo muy necesario sabiendo que aunque no sea sencillo sí es posible euskadi aspira a la igualdad real de mujeres

y así lo demuestra una y otra vez es una demanda de la sociedad vasca en su conjunto una sociedad con un movimiento feminista efervescente activo reivindicativo y siempre propositivo al que repito debemos tener muy en cuenta porque es de justicia para todas las mujeres

de la sociedad vasca para las niñas adolescentes jóvenes adultas y mayores

con gestos mínimos cotidianos u organizadas contribuyen al vivir mejor a la convivencia democrática a la sostenibilidad de la vida de todas y todos a la construcción de una sociedad más igualitaria más democrática

más inclusiva y más justa este parlamento tiene que ser una caja de resonancia de las demandas de la sociedad así ha sido en este año que cerramos

a la altura de las demandas de la ciudadanía en general y de la mitad de la población vasca en particular en este tiempo hemos hecho control y seguimiento

apoyado y acompañado otras todo con el objetivo de llevar a delante el compromiso que asumimos hemos vivido debates intensos y hemos tenido pequeños y profundos desacuerdos y los seguiremos teniendo pero hoy quiero poner en valor todos los acuerdos y avances que hemos podido impulsar con trabajo constante y persistente en las diferentes comisiones ponencias plenos con propuestas

de igualdad y de erradicación de las violencias en relación con la educación la seguridad la justicia

el trabajo la salud el empleo la empresa el autogobierno la fiscalidad la legislación

la agenda de la igualdad es la agenda de todas y de todos y continuaremos trabajando para que se instale en un lugar central del quehacer cotidiano de este parlamento y del gobierno vasco de forma definitiva y para no retroceder

que hoy nos convoca relativa a información y violencias machistas en la justificación de la propuesta recordábamos que el veintitrés de febrero el parlamento aprobó incluir en el calendario legislativo la elaboración de la ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres con el compromiso de priorizar la tramitación previa

legislativo de la once legislatura un documento de trabajo que guía la acción legislativa del gobierno vasco durante los próximos cuatro años entre los proyectos

la proposición de ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres en este contexto y con un proceso para la elaboración de una nueva normativa abierto

fiable y comparable para diseñar y realizar seguimiento y evaluar las políticas públicas la medición de las distintas formas de violencia es un desafío para el diseño en

se requiere de datos fiables y comparables que nos permitan orientar las reformas legislativas y políticas hacia una propuesta cada vez más ajustada así como monitorear y evaluar los impactos de las mismas para medir la violencia los estados cuentan principalmente con dos herramientas la primera

la segunda son los registros administrativos de los servicios públicos en euskadi toda la administración pública trabaja con registros administrativos cuando se trata de violencia en la actualidad una de las fuentes más consultadas para conocer datos oficiales

son los informes y memorias publicadas desde el departamento de seguridad revisando las estadísticas delictivas publicadas en la

y la memoria delincuencial de la comunidad autónoma vasca dos mil dieciséis presentada por el departamento de seguridad en la comisión de instituciones seguridad y justicia

que representan manifestaciones de violencias machistas bajo términos y categorías diversas malos tratos en el ámbito familiar malos tratos habituales en el ámbito familiar agresiones sexuales violencia doméstica violencia de género

lesiones categoría esta última bajo la que se están registrando casos de violencias machistas en el ámbito familiar según reconoció la consejera y esto

todas sabemos que emakunde también publica informes en el análisis e interpretación de datos estadísticos trabajan en base a información facilitada por el departamento de seguridad y en la página web del instituto se pueden encontrar estadísticas sobre lo que denominan víctimas mortales por la violencia contra las mujeres

por lo que nos quedan fuera del análisis aquellas mujeres que han sido asesinadas por desconocidos o por familiares o aquellas que por ley

no están reconocidas como víctimas de violencia de género quedan fuera del análisis un número muy importante de casos de violencia machista y señorías

si acudimos a otras fuentes como la página web de la iniciativa feminicidionet nos encontramos con que los datos oficiales y los que se generan desde la sociedad civil presentan diferencias significativas las segundas trabajan con una visión mucho más global reconociendo las múltiples formas de violencia

información mucho más cercana a una realidad de esta vulneración estructural y sistemática de nuestros derechos en las últimas décadas la terminología también vinculada a este fenómeno de la violencia contra las mujeres ha proliferado y se ha extendido de forma heterogénea cada concepto representa diferentes marcos interpretativos causas explicitas y alcances para la comprensión y abordaje de esta problemática

de datos fragmentados y que responden a visiones e interpretaciones que en algunos casos incluso se superponen o contradicen entre sí también

subregistro de situaciones como ya he adelantado cuando mencionaba el trabajo el departamento

que hay denuncias de episodios de violencia machista que se diluyen bajo la categoría de lesiones y si vamos

que solo se publican aquellas que se han perpetrado por autores de fuera del ámbito familiar

supone una dificultad para obtener una visión muchísimo más global y una dimensión mucho más cercana a la realidad del fenómeno de las violencias machistas nos quedan invisibles el conjunto de violencias interrelacionadas y distintas modalidades del feminicidio no podemos analizar el continuum de violencias y en consecuencia difícilmente podremos diseñar

de las políticas de forma integral e integrada si tenemos una

impulsaremos también políticas parciales y fragmentadas y esto hay que cambiarlo estas son algunas pinceladas del motivo por el que debemos repensar y producción de datos desde la administración pública y el motivo por el que presentamos esta iniciativa por todo ello desde elkarrekin podemos traemos esta propuesta orientada a corregir ese déficit para contar con estadísticas que representen más y mejor la realidad

y recomendaciones de convenciones tratados protocolos y comités internacionales de los últimos años que estén alineadas con marcos interpretativos y paradigmas de análisis

para ello consideramos que es urgente rediseñar el procesamiento de los datos para obtener estadísticas pertinentes

esta iniciativa es otro paso hacia adelante en este tiempo de cambio que nos ha tocado y que debemos afrontar con responsabilidad reitero que estamos muy satisfechas
gracias a todas por los esfuerzos eta eskerrik asko eskerrik asko arana

señora presidenta buenas tardes ya a todos pues

es verdad que las distintas instituciones llevamos trabajando en políticas de igualdad y llevamos trabajando en medidas

eviten y que castiguen la violencia contra las mujeres pero es verdad que tenemos que reflexionar

uno el de una persona que compareció en comisión víctima de violencia psicológica y que decía que si ella tuviera que volver a denunciar no lo haría y eso no se puede consentir de la misma manera que tampoco nos podemos permitir cartas como la hija de ana orantes que

no hemos avanzado nada es verdad que no es cierto que no

pero que una víctima una superviviente como se llama ella a sí misma tenga esa sensación nos tiene que hacer reflexionar de que tenemos que implementar todas nuestras políticas y rediseñarlas porque tal y como dice la proposición

dentro del programa legislativo de este gobierno está el proyecto de ley para la

que esta ley es importante y por eso nosotros solicitábamos que se remitiese cuanto antes porque vendrá a reforzar las actuaciones que ya se están realizando desde todos los ámbitos políticos social e institucional que lo decía claro que se han hecho muchas cosas se han hecho actuaciones se están realizando desde múltiples instituciones y

en la atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y violencia sexual

que tiene como fin la coordinación entre las instituciones implicadas en atención a las víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales para que se les garantice una protección integral sanitaria policial judicial y social y hay que destacar también que con un importante consenso

el pacto de estado contra la violencia de género a partir de comparecencias de expertos víctimas de violencia de género y organizaciones de la sociedad civil se arbitraron una serie de medidas que fueron dialogadas y negociadas

de la subcomisión y que abarcaban un amplio espectro de actuaciones tanto en la esfera judicial como educativa servicios sociales para alcanzar la erradicación del maltrato un pacto que tiene respaldo económico cifrado en mil millónes de euros de los que se ha destinado una partida de doscientos en los presupuestos de dos mil dieciocho

se haría un decreto que permitiese liberar dicha cantidad y en ese pacto de estado se habla también de la recogida de datos y de la importancia de obtener

estadísticos detallados y secuencias con la periodicidad que se establezca en su caso e impulsar la

indicadores específicos por ejemplo para conocer el número de niños y niñas menores que han sido víctimas o para personas con diversidad funcional que han sido víctimas de este tipo de conductas y también se plantean por ejemplo pedir al consejo general del poder judicial una unidad específica de evaluación de los datos procedentes de los juzgados de violencia sobre la mujer y como también

la señora arana es necesario esa medición de las distintas formas de violencia contra la mujer es imprescindible

de las políticas públicas dirigidas a la prevención y a dar respuesta a esas víctimas de mujeres pero para llevar a cabo eso es necesario contar

que permitan ver hacia dónde dirigir las medidas legislativas y las medidas ejecutivas de los gobiernos si las que ya se han realizado son suficientes son adecuadas

estas medidas por eso ese primer punto de ese estudio diagnóstico

diagnóstico con perspectiva de género desde un marco interpretativo feminista a través de ese grupo que ya existe que depende

pues nos parece nos parece adecuado porque verdaderamente la recogida de datos no es fácil

la propia definición del termino de violencia contra las mujeres debe de ser un término común a todos porque las terminologías que utilicemos todos y todas deben de ser las mismas

incluya a todas las formas de violencia ejercida

y por ello cabría empezar por una definición de violencia contra la mujer y yo he partido por ejemplo en

que define como violencia contra las mujeres aquella que es una violencia estructural que se manifiesta en todos los contextos de las vidas de las mujeres escolar laboral social política familiar

psicológico sexual físico moral y utilizando medios físicos verbales gestuales electrónicos u otros pero estos conceptos es verdad que van evolucionando

deben ir acompasados a esa evolución por ejemplo en el pacto de estado contra la violencia de género la definición de violencia se amplía ya no se considera solo la ejercida por parejas o exparejas

de estambul y se incluye además de la física psicológica y sexual la violación la mutilación genital femenina el matrimonio forzado el acoso sexual y el acoso por razones de género el aborto y la esterilización forzada

como he dicho yo y también se ha dicho por la señora arana el concepto que vamos manejando es un concepto que va evolucionando un concepto diferente y que por lo tanto los indicadores pues tienen que ser modificados por lo tanto ese sí ese segundo punto en esa enmienda de transacción a la que se ha llegado de

acorde con esas nuevas definiciones que estamos realizando también nos parece

también lo vamos a apoyar la propia emakunde pone en sus documentos el acento en la dificultad que tiene el registro de estos datos en su informe ofrece pues datos relevantes del año dos mil dieciséis y del primer semestre del dos mil diecisiete proporcionados por la división de estudios análisis de la

y de casos de violencia contra las mujeres que se registran oficialmente y es bueno decir estos datos porque como se decía los datos hay que ponerlos encima

que un total de tres mil setecientos setenta y cuatro mujeres fueron víctimas de violencia en nuestra comunidad

otras setecientos cuarenta y seis fueron víctimas de violencia por parte de algún otro hombre de su familia y doscientos treinta y uno mujeres más violencia sexual fuera del ámbito familiar y los datos del primer semestre de dos mil diecisiete reflejan que se han incrementado en casi un seis por ciento

de violencias y también el consejo general del poder judicial dice que en el tercer trimestre se han incrementado un veintinueve casi un treinta por ciento en las denuncias siendo

emakunde señalando que la fuente que yo acabo de nombrar es la más bueno de las más importantes para cuantificar esa violencia ejercida contra las mujeres

que estos datos reflejan solo una parte del problema de la violencia contra las mujeres ya que no recogen la realidad de aquellas mujeres que no se han acercado a las instituciones

en los registros mujeres que no han denunciado o que

etcétera por ello la propia emakunde suele completar la visión sobre el panorama actualmente existente elaborando otro informe complementario a este que es publicado a finales de año y que lo que hace es recoger datos de otras fuentes secundarias como se ha dicho aquí encuestas investigaciones estadísticas etcétera nos parece adecuado que nos planteemos como institución recoger todos los datos todos los datos que recojan todas las instituciones que eso se sistematice y que eso nos permita tener una fotografía completa de todos los casos que se producen en nuestra comunidad autónoma de violencia contra las mujeres porque de esa manera y con esa información podremos implementar las políticas que como digo yo creo que son necesario implementar para que no haya ninguna mujer que diga

y para que en un futuro ninguna persona superviviente de este tipo de violencia diga las cosas siguen igual con lo cual nosotros apoyaremos

de control yo desearle a todas y también a todos una feliz navidad y un feliz año dos mil dieciocho muchas gracias eskerrik asko

hain zuzen feminicidio en euskadi y nafarroa

sí gracias presidenta debatimos hoy la proposición de ley

violencias machistas y en concreto se propone la realización del estudio diagnóstico con perspectiva de género y la revisión del sistema de indicadores de violencia machista que se utilizan en la actualidad quiero expresar la satisfacción de los socialistas

se ha llegado en la enmienda transaccional firmada entre el grupo

elkarrekin podemos y el grupo eh bildu desde el origen de la propuesta veíamos la posibilidad de ratificar este tipo de acuerdos amplios

que están siendo la marca de esta legislatura y específicamente en esta

hemos tenido alguna agria discusión hace no mucho tiempo pero creemos sinceramente y lo décimos con convicción que cuando hablamos de víctimas de cualquier delito nuestra responsabilidad a la hora de debatir es pensar en ellas en este caso

y la agresión para los socialistas es muy importante que desde el legítimo derecho a la discrepancia ellas sepan que sus instituciones

les tenemos en nuestra agenda permanente y que estamos volcados con convicción en combatir su sufrimiento tenemos aquí experiencia suficiente en abordar cuestiones relativas a otras víctimas como para saber que azuzar las diferencias cuando se comparte lo fundamental

así que vaya por delante que los socialistas queremos trasmitir una vez más a esas mujeres

las causas mismas de esa violencia recientemente hemos debatido en este pleno sobre violencia machista en concreto hace poco en el pleno del veintitrés de noviembre y se pusieron unos deberes ya para el gobierno vasco para el año que viene para que se remitiera con carácter prioritario el proyecto de ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres

primer periodo de sesiones del dos mil dieciocho tenemos deberes

que viene y en este debate hicimos referencia a cifras de casos que sufren violencia machista que hoy no voy a

los expusimos los expuse aquí hace poco pero es importante

contra la violencia sobre las mujeres para los socialistas es fundamental garantizar la igualdad

y que incluye más de doscientos medidas para seguir avanzando en la erradicación de la violencia de género y donde se pone de manifiesto

las estadísticas y los datos obtenidos para poder trabajar sobre los mismos dentro del informe elaborado por la subcomisión del pacto de estado de violencia

en el congreso de los diputados se señala que desde la creación del observatorio contra la violencia domestica y de género del consejo general del poder judicial y el observatorio estatal de violencia sobre la mujer junto a los registros

del ministerio del interior o los datos de la fiscalía especial

se ha puesto en evidencia que la recogida de datos nos permite identificar realidades hasta ahora ocultas y evaluar la respuesta institucional de una manera más fiable y aunque estos instrumentos no permiten conocer las causas de las anomalías en la respuesta institucional

que deben poner en alerta las instituciones que los sustentan

en sus consecuencias no obstante tenemos que decir que en esta materia no partimos de cero dentro de nuestra comunidad autónoma el tres de febrero del dos mil nueve el segundo acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a mujeres víctimas de violencia del maltrato en el ámbito doméstico y violencia

acuerdo institucional de dos mil uno a las modificaciones normativas que se habían aprobado a nivel nacional así como completar protocolos acuerdos de colaboración y otros tipos de instrumentos jurídicos

firmantes y protocolos de intervención en los ámbitos sanitario policial judicial social educativo y de los colegios de abogados

cada año la comisión de seguimiento del acuerdo institucional

se elaborara un informe de seguimiento y evaluación donde se recogieran las acciones realizadas por cada institución y se creaba el grupo de sistemas de información dependiente de este segundo acuerdo interinstitucional

mínimos a recoger en los citados informes además hemos contado con el observatorio de violencia machista contra las mujeres que han trabajado sobre los datos

contribuir a la base de datos del observatorio estatal de violencia sobre la mujer desde luego a juicio de los socialistas vascos los indicadores

ha de ser el más homogéneo posible con el fin de que puedan compararse con más facilidad los datos obtenidos

resto de datos obtenidos a nivel estatal yo creo que en la enmienda transaccional que hemos firmado hoy que

porque en el principio no se pone el parlamento vasco insta al gobierno vasco eso es una errata pero bueno se corrige pero

a realizar el estudio diagnóstico con esta perspectiva de género a través de este grupo de sistema de información incluido entre el segundo acuerdo interinstitucional para la mejora

sobre el registro de datos y procesamiento de datos que realizan todos los agentes que intervienen en los procesos tanto de prevención

de las múltiples manifestaciones de violencia machista y además actualizar este sistema de indicadores de violencias machistas gestionado

indicadores de violencias en consonancia con el desarrollo normativo de los últimos años para todos los agentes que intervienen y que además este proceso sea liderado por emakunde con el fin de disponer de ese instrumento y tener una visión más global y permanente y además implementar este sistema y realizar ese seguimiento

publicando todos los agentes que intervienen en los procesos de prevención y protección

monográfica yo creo que el utilizar indicadores homogéneos revisar los actuales

más clara a la hora de obtener y comparar los datos que es importante a la hora luego de valorar las medidas que se consideren necesarias adoptar para seguir avanzando en el ámbito de la violencia de género

para revisar esos indicadores antes de realizar estos informes diagnósticos

que siempre es positivo y va en la línea de lo marcado en el convenio de estambul respecto de la recogida de datos estadísticos por tanto pues para finalizar este último pleno congratularnos con

a favor el partido popular del mismo como ha manifestado ya y por mi parte para finalizar desearos a todos y a todas unas felices fiestas

neurriak hartzen el segundo acuerdo interinstitucional que también ha sido mencionado anteriormente recoge la violencia contra las mujeres en tres ámbitos

en el entorno familiar y luego habla de una violencia sexual fuera de estos dos ámbitos y es posible que esto también haya que revisarlo porque quizás

algunos casos que sí pueden ser calificados como violencia contra las mujeres pero que luego no se actúa ante ellos quizás

la comisión de seguimiento de este acuerdo interinstitucional decidió en dos mil trece crear un grupo de trabajo que se conoce como el grupo de sistemas de información para que se pudieran unificar las recogidas de datos de todas aquellas entidades o agentes que atienden

en la transaccional un poco la implicación de todos los agentes y que no se concretara tanto en el departamento de seguridad aunque es cierto que la propuesta original de elkarrekin podemos

del grupo de sistemas de información porque además yo creo que es la facilitadora principal

se utiliza los objetivos del grupo también son claros analizar y difundir características causas y consecuencias de las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres en euskadi que se realicen luego diagnósticos que permitan también identificar situaciones de esa violencia contra las mujeres y que se evalúe luego la eficacia

que se ponen también al servicio de esas mujeres se acordaron dentro de ese grupo de trabajo unos indicadores mínimos que están en unos cuestionarios disponibles también en la página de emakunde en el dos mil dieciséis ya se recogieron los datos por primera vez de manera

y emakunde ya ha elaborado un informe con dichos datos en el dos mil diecisiete el departamento de seguridad también cumplimenta los datos del dos mil dieciséis que se publicará

y bueno pues además de estos trabajos que le compete realizar como miembro de este grupo el departamento de seguridad a través de la dirección de coordinación de seguridad concretamente de la división de estudios y análisis envía mensual semestral y anualmente

sobre violencia que sufren las mujeres y emakunde también pública mensualmente la valoración

de esos datos entonces bueno se están haciendo cosas pero es cierto

pretende avanzar mejorar y creo